hain zuzen ere beraz txertoa hartu ez dutenek oraindik posible dute la campaña de vacunación antigripal dos mil diecinueve

sin embargo le puedo adelantar que si comparamos los datos de vacunación de la población diana correspondientes a las primeras ocho semanas de campaña

que en dos mil dieciocho esto supone que hemos vacunado un dos por ciento más este año frente al pasado por estas fechas un total de trescientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete personas

le diré también que este año respecto al dos mil dieciocho hemos incrementado un trece por ciento el número de dosis administradas así

se han vacunado contra la gripe por lo tanto hacemos un primer balance positivo respecto a la respuesta de la sociedad vasca

en este sentido me gustaría recordar que vacunarse

y hoy en día por su seguridad y eficacia la vacuna es la herramienta más eficaz para combatir la gripe y evitar las complicaciones que esta enfermedad puede causar en las personas más vulnerables por ello quisiera aprovechar para insistir en la importancia de la vacunación de todas aquellas personas

que no se hayan vacunado todavía pueden acudir

a su centro de salud y se les administrará la vacuna añadiré que la actividad gripal de euskadi ha experimentado esta semana un ligero incremento

aunque hasta la fecha está muy por debajo del umbral epidémico

se sitúa en cincuenta y cinco coma siete casos

sin embargo desde el inicio de la temporada se han notificado ya un total

de los que catorce cumplen criterios de gravedad en concreto hasta la fecha han fallecido tres personas entre los casos graves

el último informe de la red de vigilancia epidemiológica médicos vigía del departamento de salud

que como saben analiza semanalmente la actividad gripal en euskadi asimismo este año también

para poder atender con todos los recursos tanto personas como materiales las necesidades y demandas de la sociedad vasca azkenik gripeari

no existen cauces no nos proporcionan cauces para que esto sea así

de una negociación solo si se ha configurado previamente un poder social y un poder político que le dé cauce

y esto solo lo podemos hacer entre los que reconocemos la existencia de este pueblo y entre los que reconocemos que este pueblo tiene derecho a decidir y quisiera saber dónde está usted

ahora mismo probablemente no hay estado para plantearlo pero pensar que situando el derecho a decidir en un plano sin efecto jurídico o

y lograr acuerdos con formaciones unionistas nos va a permitir salir del bloqueo en el que estamos desde nuestro

si renunciamos a nuestros derechos si renunciamos al derecho a decidir no habrá posibilidad de establecer una estrategia nacional desde el punto de vista político ni desde el punto de vista social es una hoja de ruta que nos da una fortaleza ante el estado y además es la hoja de ruta

que la prometió su partido euskal herria bildu y también elkarrekin podemos enarboló la bandera del derecho a decidir

trabajan con ahínco porque saben que está en juego su futuro eta testuinguru honetan espainiako estatuaren

altura de miras y visión para aprovechar el nuevo tiempo porque mi pregunta es están dispuestos ustedes a renunciar a la mejora de autogobierno

con una propuesta que no tenga viabilidad y recorrido institucional están dispuestos a aprobar una propuesta para dejarla en un cajón primando

esta es la ponencia de autogobierno y nos corresponde responder al deseo mayoritario de actualizar y profundizar el autogobierno vasco más es mejor pacto y desde la perspectiva política espero que se sumen voluntades a la apertura de un nuevo tiempo un tiempo de pacto
que suponga el reconocimiento de la realidad nacional propia y la asunción de la plurinacionalidad del estado eskerrik asko eskerrik asko

akordioa yo creo que hay tres circunstancias que marcan la segunda mitad de dos mil diecinueve y condicionan las políticas de dos mil veinte

la posibilidad de una crisis económica en la que toca

y por último una incertidumbre política que deriva en una demanda ciudadana de llegar a acuerdos de llegar a consensos

más allá de la valoración del acuerdo en sí y de la impronta que elkarrekin podemos ha dejado en estos presupuestos

el papel de la oposición en un momento de complejidad política y en un momento de complejidad económica extraordinaria el mundo que evoluciona con rapidez

como un problema y no como una solución a sus problemas eta elkarrekin podemosetik aukera bat egin dugu oposizio eraikitzaile bat egitea

que habrá noventa y dos profesionales más en la atención primaria

que se creará más y mejor empleo sobre todo para las mujeres que no se dejar caer a empresas viables que la transición energética y la lucha contra el cambio climático

en las personas y que se ponen en marcha medidas muy demandadas para la protección y mejor atención a las mujeres víctimas de violencias machistas y de la misma manera puedo decir claramente que nuestro objetivo seguirá siendo la gratuidad en la educación de cero a tres años frenar las degradaciones de los servicios públicos especialmente en sanidad y educación públicas

y que la reforma del sistema de garantía de ingresos tiene que ser más garantista más justo y tener perspectiva de género

solo con lo conseguido seguiremos trabajando para que euskadi avance al ritmo que se merece transformando y dando estabilidad a nuestros sectores productivos

asegurando la igualdad de oportunidades y tomando decisiones que nos permitan decir con orgullo que trabajamos para solucionar los problemas
y no para perpetuarlos eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

tanto por su contenido como por la forma en que sea alcanzado desde el punto de vista del contenido usted ha hecho referencia a algunas cuestiones se ha producido

para evitar toda violencia machista favorecer la conciliación reducir la brecha salarial o impulsar una mayor incorporación de la mujer al mundo laboral acompañar la lucha contra el cambio climático con una transformación del modelo productivo e industrial impulsar las oportunidades de la denominada economía verde

incrementar las ayudas a las personas que más lo necesitan y aportar más recursos de los previstos a la renta de garantía de ingresos dotar de mayor a los planes de empleo atendiendo a la juventud la incorporación de la mujer y las personas paradas de larga duración asumir el compromiso de mejorar la calidad

primar atención primaria y educación infantil elkarrekin podemos ha subrayado estas prioridades que tendrán su traslación al presupuesto dos mil veinte y estoy convencido también a las propuestas presupuestarias de los próximos años destaco por lo tanto la aportación en contenidos

también la forma y reconozco que la actitud de elkarrekin podemos y agradezco esa forma de negociar de elkarrekin podemos en este caso

con auténtica voluntad de acuerdo se ha aplicado el realismo y la responsabilidad compartida desde partidos que sustentan a un gobierno como también un grupo parlamentario de la oposición se ha aplicado desde el mes de julio con las directrices económico presupuestarias que explicamos a todos los grupos parlamentarios

de elkarrekin podemos orientada al acuerdo ha facilitado el fin deseado euskadi contará con un presupuesto aprobado y podremos seguir avanzando en el modelo que suma desarrollo humano y crecimiento sostenible beraz ziur nago lehen urrats horrek

afortunadamente en los últimos meses hemos tenido alguna buena noticia que otra

ganó las últimas elecciones generales la segunda es que el partido socialista llegó a un acuerdo con unidas podemos para conformar gobierno

todos nosotros en un espíritu pactista también se ha llegado a un acuerdo con elkarrekin podemos para tener presupuesto en euskadi y esto es una noticia

que este gobierno va a tener un nuevo presupuesto y eso va a permitir que este gobierno consolide su programa de gobierno y dé un nuevo impulso a las políticas sociales que desde las diferentes consejerías se pusieron en marcha a inicio de la legislatura como los programas que están inmersos dentro del plan director de vivienda dos mil dieciocho dos mil veinte

que está incluido o que está dentro del marco de la ley de vivienda aprobada en el año dos mil quince una ley de vivienda que

una clara preferencia a las políticas de alquiler en este país un plan director de vivienda que pretende ofrecer soluciones adaptadas

colectivos como es el caso del colectivo jóvenes la preferencia de este gobierno en el caso de las políticas que ha impulsado el señor arriola desde el departamento de vivienda son primero dar preferencia a las políticas de alquiler y segundo dar preferencia a colectivos como decía como son

planes que permitirán a través de los apartamentos dotacionales en alquiler social que esos jóvenes tenga la posibilidad de emanciparse o como el programa

de favorecer precisamente esa emancipación juvenil concediendo ayudas directas para pagar parte del precio del alquiler a través de la orden del dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho que puso el uno de enero en marcha este programa en julio a la vista de los resultados

que arrojó este programa usted señor arriola introducir una serie de cambios con el objeto de flexibilizar esos requisitos y permitir un mayor acceso a los jóvenes a este programa por tanto yo hoy le pregunto cuándo van a ser efectivas las modificaciones previstas en el programa

que las ayudas al alquiler lleguen a un mayor número de personas jóvenes eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna

después de un año de vigencia del programa lo que nos ha permitido chequear sus medidas y sacar conclusiones en base a la experiencia

van a ser efectivos ya desde el próximo miércoles día dieciocho

esta semana por el consejo de gobierno quiere esto decir que desde esta fecha un número considerable de aspirantes que se quedaban fuera con la regulación anterior van a poder optar

de las personas jóvenes los cambios que se introducen son por una parte el mínimo de ingresos ya no se sitúa en el importe de la renta garantía de ingresos sino en tres mil euros anuales

a un alquiler social por otra parte el límite superior se eleva de quince mil a dieciocho mil euros en el caso de solicitudes individuales

para unidades familiares y familias numerosas respectivamente de esta forma se incluye a un ámbito más amplio de la población joven y se atiende a las realidades ya detectadas por alokabide

asimismo se ha reducido la edad mínima

a dieciocho años igualándola a la que se contempla en otros programas municipales de ayuda al alquiler en euskadi

las personas jóvenes que se emancipan a una edad más temprana cumpliendo los demás requisitos y además se soluciona el problema de las parejas en las que uno de los miembros no llega a veintitrés años y quedaba excluido de la ayuda el resto de los requisitos no cambian el tope de edad sigue siendo treinta y cinco años el importe máximo de alquiler se mantiene

o del sesenta por ciento en el caso de que sea un piso compartido con un tope de doscientos cincuenta euros mensuales por cada ayuda concedida lo mismo que la prestación económica de vivienda o la prestación complementaria de vivienda

a primeros de este mes se habían presentado al programa gaztelagun un total de mil seiscientos dos solicitudes

y cuatrocientos cuarenta y cuatro se habían denegado de estas últimas

en un setenta y seis por ciento y la edad en un cinco por ciento de los casos estimamos que con los criterios más flexibles introducidos una parte

podrán acceder a las ayudas y que se sumará también un número considerable de personas que no han llegado a presentar su solicitud porque sabían de antemano que no reunían los requisitos económicos o de edad previstos en el programa

de este año más de ochocientos personas jóvenes se habrán beneficiado de esta ayuda para emprender un proyecto de vida autónomo

porque se trata de un colectivo sensible que hasta el momento no había podido acceder a las ayudas de vivienda esperamos que con la flexibilización de los requisitos la cifra de solicitudes se incremente sustancialmente y que el porcentaje de resoluciones favorables llegue como mínimo al ochenta por ciento

en línea con los objetivos cuantitativos previstos por el gobierno

buenos días señorías señores miembros del gobierno señor lehendakari yo vengo a coincidir en la pregunta con la que le ha formulado su nuevo socio de manera que ya estoy

el acuerdo me parece normal que lo valore usted así desde su posición política no así para el conjunto de la sociedad vasca ni tampoco es nuestra posición tiene usted todavía tiempo para seguir explicando las bondades de este acuerdo de presupuestos pero quisiera trasladarle algunas inquietudes que nosotros tenemos al respecto también al hilo de lo que ha sido el debate esta mañana tengo la ventaja de que me toca cerrar esta primera ronda

señor martínez que después de tres años ha llegado a la conclusión de que el papel de la oposición es el de apoyar al gobierno yo

no le voy a desmentir al señor martínez porque es de muy mala educación pero no le creo tampoco

hayan cambiado radical sensiblemente de posición respecto de las cosas que dijeron de podemos las acusaciones de populismo barato

ni que ustedes sinceramente piensen que el icono de los nuevos presupuestos o de este acuerdo que es el aumento de un cuatro por ciento en la rgi que se acumulan los aumentos

el modelo social que propone podemos sea el más conveniente también para la evolución del empleo de la economía en el país vasco yo no creo que ustedes hayan

le diré sin nada más que usted es víctima de sinceridades sucesivas son distintas según va pasando

y es que los nuevos socios tienen algo que él no tiene tienen un voto más y por tanto estos nuevos socios pues dan la mayoría cosa que el partido socialista no da

y dice que la epidemia de pactismo de que somos objeto en esta cámara es consecuencia de un acuerdo en madrid entre el partido socialista y podemos y si lo dice ojo que si usted tiene presupuestos es porque

de autodeterminación y de decidir que plantean estos señores de enfrente se decide en madrid y que ustedes si tienen presupuestos aquí es porque hay un acuerdo en madrid

que es el apoyo a las políticas que impulse un presunto gobierno del partido socialista con podemos en la liquidación de la reforma laboral en incremento

que anticipan en palabras del señor martínez una nueva crisis económica me gustaría saber si hay un acuerdo más profundo y si los pactos que hoy le favorecen a usted

a mantener determinadas posiciones en madrid como insinúa el señor andueza

lo que usted empezaba por decir que la pregunta es la misma que la que ha formulado el coordinador y portavoz parlamentario de elkarrekin podemos mi valoración

muy positiva y los presupuestos dos mil veinte serán los más sociales de nuestra historia por lo demás no entro en lo que son sus tesis

las sinceridades sucesivas que estaría bien que usted se lo aplicara también sobre las sinceridades sucesivas

sus conjeturas sobre lo que puedan ser también las consecuencias de este presupuesto o de este acuerdo presupuestario en relación a lo que es la gobernabilidad en el estado español sí le diré que nuevamente se equivoca usted en el planteamiento yo represento al gobierno vasco no soy el que negocie la gobernabilidad del estado español

a conformar gobierno serán los partidos políticos por lo tanto traslade su pregunta a los partidos políticos trasládesela usted a sí mismo también eskerrik asko

de reuniones que no sé si es para la investidura pero creo que sí para

lo cual quiero decir que de sus últimas palabras dado que ese no es su papel entiendo yo usted que no acudirá

por cosas de la vida parlamentaria y vienen las navidades y yo le voy a hacer un regalo mire le voy a regalar el libro de rajoy y le voy a pedir que lo que lo lea con atención habla de usted

habla de un esfuerzo y de una creencia real en que se puede mejorar

habla de una cosa para mí muy importante que es que habla de la lealtad

navidades y le preguntaré por sus lecturas en febrero eskerrik asko

creo que en todo caso sin necesidad de leer el libro mi memoria es mejor que la del señor rajoy

que es presupuesto dos mil veinte mire los presupuestos contemplan por primera vez un enfoque global

la transición ecológico energética en una oportunidad de crecimiento sostenible generación de actividad y empleo y esta es la prioridad y estimamos que se puedan crear once mil quinientos nuevos empleos el próximo año el acuerdo con elkarrekin podemos garantiza

y deuda en el doce por ciento del producto interior bruto refuerza la atención a los servicios esenciales de salud educación o protección social para las personas que más lo necesitan permite aumentar la inversión por encima del diez por ciento y la innovación por encima del cinco por ciento por lo tanto considero que son unos

los presupuestos son además razonables realistas y positivos para euskadi señor alonso y creo que es una buena noticia me parece que usted debería preguntarse también por qué

a la que se ha negado a la negociación de los presupuestos sabemos que vamos a tener la oposición frontal de eh bildu y del partido popular ahora bien los presupuestos no son neoliberales como dice eh bildu ni responden a una deriva soberanista

señor alonso esta semana el partido popular que gobierna madrid y andalucía ha dicho que no puede bajar los impuestos y rajoy rajoy ha reconocido que subió los impuestos ustedes dicen una cosa y hacen la contraria

de las sinceridades señor alonso la razón la conocemos porque se aplica en euskadi hasta con atender a la realidad socioeconómica

en todo caso los presupuestos dos mil veinte son razonables y realistas centrados en atender las necesidades de las personas dinamizar la actividad económica y crear empleo

hace que más personas estén trabajando y no necesiten esta ayuda este es el deseo de todas las personas trabajar

son mujeres y que casi un tercio de quienes la reciben son las personas pensionistas que más lo necesitan y esta es una inversión en cohesión social eskerrik asko

sobre comercio y exportación de armas en euskadi un informe que valoramos por lo exhaustivo en el análisis pero que también es un informe que desarrolla con gran detalle todos los aspectos que el gobierno vasco no puede implementar dice dicho informe que podemos deducir y abro comillas que conforme al análisis efectuado en materia de competencia en comercio exterior armas e industria armamentística es necesario subrayar

y la alternativa que se propone por parte del gobierno es la creación de un código de conducta y transparencia marco sobre las buenas prácticas comerciales que se aplicaría

voluntariamente remarco voluntariamente a esta iniciativa aunque el propio informe el propio informe de gobierno indica las limitaciones de estos códigos voluntarios en las empresas que los tienen por lo tanto llegados a este punto y en esta materia señor lehendakari lo que toca es no ser espectadores sino ser actores como decía el señor mayor zaragoza el martes al recoger el premio rené cassin

horretan el informe tampoco dice nada ni cuestiona

y el gobierno podría hacerlo cuestionar la política del gobierno central sobre el control de la producción y comercio de armas y denunciar la opacidad de la junta

que es la que decide qué cómo cuándo y con quién se comercia en materia

armagintza industriari euskal herritik armen ekoizpena eta merkataritza murrizteko que además tenemos una ley vasca de cooperación del año dos mil siete que menciona la coherencia de políticas entre la política de cooperación y el resto de políticas y esto se sigue sin hacer y estamos en el año dos mil diecinueve y se ratificó en un documento marco de referencia para la coherencia de políticas en el año dos mil dieciséis y repito que no se cumple

para nosotros es una desafortunada sugerencia de modificación de un artículo de una ley de la ley catorce barra dos mil siete de solidaridad con los países empobrecidos concretamente al título tres punto tres un artículo que señala que en sus políticas de promoción

el gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción comercialización o financiación de armamento este informe lo que dice es que hay que facilitar las subvenciones y deducciones de carácter fiscal a cambio de que las empresas se incorporen en ese código de conducta vuelvo a decir

que no se garantiza su efectividad lo que a nuestro entender hay que hacer con esta ley con la ley

buruz sabe que esta preocupación no es nueva para para mí ni para nuestro grupo

de armas a arabia saudí así lo reiteramos en distintas iniciativas a lo largo de toda

conjunta con eh bildu sobre la creación de un centro de empresas y derechos humanos que venía de la mano

de nuestro país una propuesta que desecharon tras haber llegado a un acuerdo la tarde

parlamentario vemos que en este informe retoman la idea un tanto descafeinada y cerrada en la composición de ese futuro centro observatorio y sin carácter

y afecte al conjunto del sistema económico ala egin dugu

buruz porque señor lehendakari para nuestro grupo la colaboración por activa o por pasiva

bélicos es algo que nos preocupa nos ha preocupado y nos va a seguir preocupando y nos preocupa y nos seguirá preocupando porque mientras aprueban leyes de cooperación que no se cumplen mientras

se cumplen mientras que se nos habla de coherencia de políticas usted señor lehendakari

vasco y encima además de ponerla ejemplo la subvencionamos y claro que es un ejemplo y es una empresa puntera

pero también pero también es la misma empresa de la que supimos hace unos días gracias a una investigación del diario punto es que mantiene la relación comercial con la dictadura saudí fabricando y haciendo el mantenimiento de los aviones que bombardean a la población de los motores de los aviones que bombardean a la población de yemen y han ocasionado miles de víctimas no sería mejor por nuestra parte redirigir la empresa hacia la aviación civil y el reto ecológico también en el sector de la aviación porque

gobierno pero no es la única empresa que fabrica componentes que luego son

tengo los datos señora tapia aquí encima de la

itp y los tengo tengo su respuesta por escrito encima de la mesa y ese es el dinero

de armas o de componentes que luego son montados en armamento egia da zenbait eskumen zailtasun ditugula esan dut

ekintza geldiarazi porque además como usted mismo señor lehendakari dijo recientemente además de la legalidad hay que tener en cuenta la sensibilidad humanista del pueblo vasco se puede dejar de dar dinero público a empresas que exporten o produzcan armamento enpresa horiei

que ha sido propuesto por agentes sociales y que se sugiere de una forma muy descafeinada en ese informe de empresas y derechos humanos para vigilar el cumplimiento de los mismos en toda la cadena de producción y además que sea vinculante y así se aprobó en cataluña y hablando de competencias ese centro no fue

constitucional o sea que no hay excusas competenciales se puede trabajar para que la coherencia de políticas sea

coherente y no la incoherencia en la que nos encontramos en la actualidad euskal azpiegiturak erabiltzea salatu daiteke nahiz eta eskumena ez izan

en otros sectores que no supongan la vulneración de derechos humanos

de calidad potente que genere empleo que genere riqueza pero que también sea ético kalitatezko etorkizun industriala nahi dugulako indartsua baina etikoa ere gure herrialdearentzat señor lehendakari hay mucho margen de maniobra son ustedes mismos quienes se atan las manos para no actuar

y les hemos puesto algunos ejemplos tenemos materia tenemos mucho que hacer y tenemos capacidades competencias y presupuesto para hacerlo eskerrik asko

esaten zenuen la secretaria general de derechos humanos convivencia y cooperación del gobierno vasco encargó al instituto globernance

democrática un informe específico sobre y leo el título comercio y exportación de armas en euskadi el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia el control de las exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable creo que está claro el alcance

buruz el informe tenía tres objetivos claros de acuerdo con el encargo que se había realizado y por una parte estaba el comercio de armas su exportación y medidas de transparencia y control para la no vulneración de los derechos humanos el derecho internacional humanitario y desde luego el alcance estaba bastante claro

elementos claves era el de las exportaciones de armas a países objeto de sanciones por parte de naciones unidas o de la propia unión europea y en tercer lugar el establecimiento de los mecanismos de control por parte de instituciones vascas

en esos ámbitos buscando siempre una mayor transparencia y una profundización en la dimensión de la responsabilidad social corporativa esos eran los encargos

teniendo en cuenta y usted lo ha señalado al menos parcialmente las competencias de las que disponemos por una parte del análisis de las normas jurídicas aplicables tanto desde la parte interna como de la parte del estado europea internacional en general se concluye y usted lo ha dicho bien que ni el gobierno vasco ni el parlamento vasco ni ninguna de nuestras instituciones ostenta competencia alguna

en segundo lugar del mismo modo se afirma que en materia de comercio exterior y usted este sí que lo ha dicho claramente armas e industria armamentística la constitución española sustrae

de competencia exclusiva además respecto al marco europeo el informe destaca que la unión europea es la entidad

más garantista y protectora de los derechos humanos a nivel internacional porque tiene en vigor un doble mecanismo garantista por una parte tiene

y por otra parte de la carta de derechos fundamentales de la propia unión europea controlada por el tribunal de justicia de la unión europea al que pueden acudir todos aquellos que consideren que existe una potencial vulneración en cualquiera de las materias citadas dentro de este marco general

concreto posible donde el papel de las instituciones vascas en relación a los operadores empresariales vascos del sector queda perfectamente

orientada sobre todo a lograr esa mayor transparencia y un aumento de la responsabilidad de nuestras empresas propone el diseño o creación

de un código de conducta y transparencia marco para las buenas prácticas comerciales se aplicaría a todas esas empresas vascas del sector y se deben adherir voluntariamente

y en opinión de los auditores además se podría creo de los autores

ese observatorio de derechos humanos y derecho humanitario en general

de conducta que deben seguir todo este tipo de empresas para el comercio integrada por representantes de administraciones públicas sector privado empresas del sector evidentemente clientes y sociedad civil en general en todo caso

lo siguiente para poder proyectar en el futuro lo establecido en el marco normativo compuesto por la ley diecinueve barra dos mil trece de nueve de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno sería necesaria la modificación de la ley cincuenta y tres barra dos mil siete de veintiocho de diciembre sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso

el reglamento de control de comercio exterior de material de defensa de otro material y de productos de tecnologías de doble uso a la vez que debería igualmente ser modificada la ley de secretos oficiales que es la ley nueve barra mil novecientos sesenta y ocho de

que buena parte de la capacidad de iniciativa en este ámbito está en el poder legislativo y en el poder ejecutivo del estado español

pues por la parte que en el futuro inmediato pueda tocar a su formación política en las responsabilidades tanto legislativas como ejecutivas en el ámbito estatal donde se pueden establecer diferentes tipos de iniciativas que realmente tendrían impacto en las leyes

en cualquier caso en relación a los códigos de conducta y a las medidas que podría tomar el gobierno vasco el informe constata que son pocas las que son pocas las empresas del sector armamentística que disponen de ese código de

y de un código de conducta en definitiva transparente y abierto por tanto desde ahí también tenemos actuaciones que llevar a cabo y hasta aquí por aclarar cuál es el contenido del informe porque creo que es relevante a partir de ahí

es promover la aplicación de los máximos estándares de transparencia en el seguimiento y control de las exportaciones de armas además además es un imperativo que tenemos que llevar adelante es un imperativo normativo y en la medida que contribuye a la seguridad

es la primera de las actuaciones que vamos a emprender además los organismos internacionales tanto establecidos a nivel europeo como a otros niveles

para actuar y por este motivo el gobierno vasco además va a seguir trabajando por garantizar esa transparencia y el respeto a los principios internacionales en materia de derechos humanos es nuestra intención abordar el próximo año la elaboración de un plan de empresa y derechos humanos plan que incluirá contenidos en materia de comercio de exportación de armas

internacionales de derechos humanos como no puede ser de otra manera y este plan requerirá un amplio esfuerzo de participación de instituciones empresas y desde luego entidades de la sociedad civil que deberán tomar parte también en el establecimiento del mismo

esta actuación va en línea perfectamente con lo que es el marco de referencia para la coordinación y la coherencia de políticas públicas que usted también ha señalado además

en el programa de gobierno y usted lo puede leer en el compromiso

por tanto la aplicación de los máximos estándares de transparencia seguimiento y control de las exportaciones

y una vocación de este gobierno la iniciativa de encargar y presentar este informe parte desde luego del gobierno y

y desde luego resulta cuando menos sorprendente porque

para conseguir la garantía de establecimiento de la máxima transparencia en esa exportación dentro como siempre del ámbito competencial

a este ámbito pero desde luego no quiero dejar pasar la ocasión porque usted ha hecho referencia a una empresa y me hablaba de subvenciones directas nunca ha recibido una subvención directa otra cosa es que en los programas de concurrencia competitiva

y principalmente no sobre todo y principalmente no cien por ciento en investigación en aviación civil y usted lo sabe perfectamente

señora tapia y señor lehendakari que era a quien dirigía

a estas preguntas que usted lidera este informe porque es de una secretaría que está

señora tapia le vuelvo a decir usted ha relatado una serie de competencias y yo le voy a relatar que tenemos la competencia y usted lo sabe mejor que yo que para

y ahí hay mucho campo de trabajo y de futuro para hacer en subvenciones en participación en empresas o en acción exterior que el propio lehendakari

realiza a veces de forma más transparente y otras que nos entramos mientras se hace el viaje como el que fue el caso aquel de arabia saudí

y en algunas cosas yo les vuelvo a preguntar que

liderazgos políticos porque si hay una coincidencia en la práctica totalidad de todos los grupos es por ejemplo en el pacto vasco de migraciones

y los grupos han aportado y hay muchísimas cosas que no son competencia del gobierno vasco que se han exigido a la unión europea al gobierno de españa estuvo el lehendakari en el vaticano y hay muchas cosas en las que no tenemos competencia no se puede hacer lo mismo en el resto de los temas o solo se puede

diferente a las competencias que tenemos en base a la opinión del gobierno en base también a si el parlamento por ejemplo lo considera

tan claro y además contradice bastante esa

consensuado en el pacto vasco de migraciones por el diálogo por la convivencia con mantener una apuesta decidida

del armamento y de la guerra en euskadi porque no estamos diciendo que todo esto se cierre de un plumazo de aquí a mañana sino de que se transforme se transforme

mayor zaragoza cuando hablaba el otro día de si vis pacem para bellum tenemos que pasar al si vis pacem

son las armas para el diálogo lo que sobran son las armas lo que hace falta es el diálogo señora tapia y las propuestas que hace el informe

voluntariedad por parte de las empresas y se han demostrado y el propio informe lo dice como totalmente insuficientes y también en el mecanismo que está generando la onu se demuestran insuficientes

insuficientes porque también el bbva tiene un código de conducta y financia

de vulneración de derechos humanos bastante grave denunciado también en un informe reciente por parte de naciones unidas por tanto lo que falta es sobre todo voluntad porque no le vamos a pedir nada más de lo que hasta donde lleguen las competencias del gobierno y en todos los demás

en el parlamento vasco para pasar de esa transformación de una industria de la guerra en una industria de la paz de calidad que genere riqueza

justa y que sobre todo no subvencionemos ni por concurrencia competitiva a empresas que

y fabriquen armas y ese plan de derechos de empresas y derechos humanos le voy a hacer una confesión señora tapia yo lo vi

hace meses y quiero saber le pregunté al señor jonan fernández hace unas semanas dónde estaba cuándo va a estar o si va a estar

no se termina de presentar y ahí había una propuesta sobre el cambio de la política de subvenciones para

en materia de internacionalización y eso está aprobado por este propio parlamento además

que ni se ha hecho ni se va a hacer entonces quiero saber si se va a hacer o no se va

una enmienda aprobada en este parlamento en ese sentido y en teoría el plan de empresas de derechos humanos también va por esa

no somos camicaces queremos transformar esa industria industria de la paz y también el centro lo queremos hacer

de carácter vinculante participado por la sociedad civil y también por las empresas

eta gure erantzukizuna da eta gure borondatea da horiek betearaztea de todas maneras en su primera intervención

y permítame la palabra de una forma un tanto demagógica el argumento del artículo tres punto tres de la carta de justicia y solidaridad

y quiero decirle con toda firmeza y claridad que cuando se acusa al gobierno vasco de colaborar con empresas dedicadas a la producción comercialización y financiación de armas se incurre y creo que no es un error en una falsedad de raíz en una falsedad que además tiene

es una falsedad de raíz porque el gobierno vasco cumple la ley también en este ámbito en todos pero también en este ámbito ni ha aprobado ni apoya

ni tiene líneas específicas de ayudas a empresas de estas características y en el caso que estábamos hablando de de inconcurrencia competitiva programas en concurrencia competitiva de investigación para proyectos de investigación que son perfectamente transparentes en ningún caso lo son para este tipo de industria porque está expresamente además prohibido y así lo tenemos recogido segundo es una falsedad de raíz porque desde luego no estamos

desde el gobierno vasco ni desde ninguna otra administración pública vasca en la capacidad de poder excluir de estas convocatorias a ningún sector de empresas si estas operan legalmente y fuera de ese ámbito armamentístico y usted

tercero también es una falsedad porque lo que se ha hecho desde el gobierno es comprometernos

esta manera encargando este informe que nos permite tener además unas líneas claras de actuación en el ámbito de la exportación de armas desde euskadi con el objetivo de mejorar esa transparencia y ese modo de actuación y ese código de conducta tenemos el marco jurídico que tenemos pero nos comprometemos a actuar el encargo del informe no se lo voy a volver a repetir pero desde luego está y nuestro compromiso y su proyección a futuro es el de encontrar un marco general de desarrollo entre instituciones empresas y sector civil en ese plan de empresa y derechos humanos que esté recogido en todos y cada uno de nuestros programas esa es nuestra voluntad y nuestro compromiso eskerrik asko

barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta buenos días lehendakari consejero

bien conocimos en la prensa que la universidad pública vasca iba a acoger una charla de uno de los asesinos de jesús velasco jefe de miñones de álava y de eugenio lázaro jefe de la policía municipal de vitoria que le va a acoger el día diez de diciembre de la mano de sare

se podía tomar por las autoridades rectorales y que semejante afrenta a las víctimas no se iba a permitir y que la convocatoria quedaría en

y esta pregunta pues se retiraría pero no fue así la ofensa

por supuesto a pesar de la petición de las asociaciones de víctimas de las familias de los señores velasco y lázaro y de muchas asociaciones más partidos medios

nosotros pensamos que usted iba a hacer algo lehendakari estábamos hablando de una institución pública que funciona con el dinero que aprueba este parlamento administra su gobierno que usted se iba a poner al escándalo de esa manera celebra la upv

insulto a los valores que representa la universidad como si se le invita al monje shaolin o a cualquier violador dirigirse a la universidad valorar

lópez de abetxuko violó el derecho a la vida

y más que eso por qué no hizo nada para impedir la infamia eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

o que contribuya a su revictimización y a partir de este principio nos corresponde deslindar el marco legal y la interpelación ética

la justicia la justicia no ha suspendido este acto porque no hay enaltecimiento del terrorismo sabe usted el pronunciamiento del fiscal de la audiencia nacional señor barrio y fue organizado por una entidad legal con la participación de personas que no tienen restringidos sus derechos desde el punto de vista legal desde la perspectiva

y reafirmo la clara posición del gobierno vasco más allá del marco legal más allá del marco legal

la universidad actuó en virtud del principio de legalidad y la libertad de expresión realizó un llamamiento

sare para que tuviera en cuenta el sentir de las víctimas de eta y actuarse con sensibilidad el día de los derechos humanos el día al que usted se ha referido afirmé que además de la legalidad debiera imperar la sensibilidad humanista como lo ha recordado también el parlamentario del grupo elkarrekin podemos el señor martínez zatón expreso mi deseo y hago la petición y propuesta de que esta controversia sirva para evitar que situaciones como esta puedan repetirse

gracias lehendakari ya sé que la conferencia se celebró

instituciones públicas usted es el lehendakari de todos los vascos sobre todo gestiona y administra a través de los presupuestos lo público no y usted lidera el plan de convivencia y derechos humanos

ustedes se hacen la foto los tres sectores usted rueda de prensa qué es eso de cara a la galería sabe lo que dice o lo que usted dice o cómo interpreta usted el plan de paz de convivencia

lehendakari solo estética y propaganda a la hora de activarlo para defender los derechos humanos y sobre todo sobre todo la memoria de las víctimas no sirve ese plan

para nada es papel mojado no activó usted lehendakari ningún mecanismo en su mano para impedir el acto de un asesino llamado lópez de abetxuko

supuestos derechos de los presos cuando él es incapaz de entender el derecho a la vida mire además estamos viendo en la upv pancartas de eta fotos de etarras

ahora charlas en la universidad en una especie de particular herenegun universitario es decir mire algunos muy jóvenes pudimos

y hoy conocemos y tenemos relación con sus familiares con sus hijos con sus hijas con sus sobrinos y nietos y les acompañamos el otro día también profesores de la upv fueron asesinados por eta es decir juan de dios doval yo era estudiante de la facultad de derecho de san sebastián profesor de procesal

consejeros del gobierno vasco en materia de universidades fueron necesitamos por eta fernando buesa y josé ramón recalde

en la dimensión universitaria que tiene y se ha demostrado que es una filfa mire la señora balluerka ha demostrado unilateralmente que el plan de convivencia y derechos humanos
algo tendrá que hacer desde luego usted para evitar la radicalización de la universidad eskerrik asko barrio jauna amaitu da denbora

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio tengo muy presente el plan de paz y convivencia como también el plan de convivencia derechos humanos

vigente en este momento tengo muy presente la ley de víctimas del terrorismo que la sigo puntualmente por lo que fue también mi responsabilidad en legislaturas anteriores como parlamentario presidente incluso de la comisión de derechos humanos y solicitudes ciudadanas

tengo muy presente por lo tanto cuáles son las competencias que me corresponden como lehendakari a la hora de evitar lo que yo pueda promover y no impedir me gustaría que todo esto que usted ha explicado aquí se lo planteará al juez

la celebración del acto en todo caso esta sociedad avanza afortunadamente hacia la plena normalización de la convivencia yo comparto lo esencial de su denuncia y la indignación sentida por las víctimas pero no creo sinceramente señor barrio una vez más que discursos desmesurados ayuden a mejorar en muchas ocasiones las propias víctimas han pedido mesura en las declaraciones públicas las cosas

están mejor y cada día lo están más aunque es cierto que algunos siguen teniendo la asignatura pendiente de reconocer el daño injusto causado

no hay vuelta atrás tengo la convicción de que lo sucedido va a servir para que situaciones como esta no se repitan la causa que defienden los organizadores del acto

más bien al contrario es posible que haya retrocedido el futuro de la convivencia

evitar hacer lo que pueda dañarle solo se trata de eso

euskadi se sitúa en el grupo de países con mayor equidad y en el límite de los que obtienen mejores resultados siendo el de mayor equidad

hemen daukazu euskadi se sitúa en el grupo de países con mejores resultados y mayor equidad junto con japón estonia dinamarca finlandia irlanda letonia o eslovenia

tenemos mucho que avanzar pero se debe reconocer el camino recorrido el ejemplo lo tenemos hoy mismo ayer y hoy mismo señora ubera

el plan para la atención del alumnado inmigrante o el informe de escolarización del alumnado de origen extranjero en euskadi unesco

la consejera de educación ha presentado en la sede de unesco por eso no puede estar hoy aquí presente la consejera de educación ha presentado en la unesco en parís nuestras políticas en este ámbito

su gestión humana y tecnológica han evolucionado mejor porque hace siete años la geolocalización de las llamadas entrantes al

porque hace siete años la telefonía móvil inteligente no estaba tan extendida porque hoy disponemos de aplicativos como la sos deiak uno uno dos de emergencias o la app de la incluso porque la red de carreteras es mejor tiene por tanto más facilidades para la

zerbitzuen inguruan gauza asko hobetu dira y si usted pretende cuestionar la mejora de los servicios por una serie de incidencias

como la del corte puntual de suministro eléctrico en el centro de coordinación de emergencias de

creo que sinceramente se confunde porque es verdad en sufrimos una serie de incidencias técnicas lo hemos reconocido lo hemos explicado lo hemos explicado en público y también en privado a personas afectadas han sido fallos técnicos insisto fallos técnicos e informáticos puntuales puntuales detectados corregidos y estabilizados porque

los planes de contingencia han funcionado y sobre todo tengo que decirle que ha funcionado el personal que atiende el servicio que es lo que realmente importa que el servicio funcione y que se sigaan atiendiendo con normalidad esas más de dos mil llamadas

a que el servicio está peor usted ha dicho es que la gestión humana y tecnológica es mejor y por lo tanto el servicio está mejor mire le voy a hablar sobre la gestión tecnológica

leo textualmente en julio se implementó un software nuevo para la recepción y gestión de las llamadas entrantes a día de hoy no se usa ya que siempre ha dado problemas

se ha sustituido el sistema de grabación de llamadas por otro que no funciona bien no nos da acceso a las llamadas grabadas en tiempo real y funciona peor que el anterior el software que habitualmente utilizamos suele dar problemas y a menudo se cuelga tenemos que pasar al de reserva

incluso hay momentos en los que cogemos las emergencias a bolígrafo y papel a bolígrafo y papel si toca un fin de semana puede que hasta el lunes no haya solución posible y tenemos que tirar estos cortes en el servicio afectan a todos sos deiak sadae osakidetza

tráfico esto es la mejora tecnológica que han tenido ustedes pero ahora voy a ir

el ochenta por ciento desde entonces el ochenta por ciento de la plantilla se ha ido se ha ido el ochenta por ciento de la plantilla

el cien por ciento es decir la gestión que han hecho ustedes del capital humano

en cuanto al conocimiento y experiencia se define por sí sola pero la calidad del servicio la calidad del servicio se define por tres parámetros cercanía precisión y agilidad cuando ustedes centralizan un servicio en bilbao en txurdinaga la cercanía pasa a mejor vida

no tiene más cerca txurdinaga de lo que tenía vitoria gasteiz o donostia san sebastián

las localizaciones erróneas se han multiplicado por cinco precisamente porque

de gipuzkoa ni el territorio de araba

qué le voy a decir el apagón del trece de octubre es el primero de los muchos que tendremos en el futuro hoy ha sido un día de temporal esta noche quiero no pensar qué hubiera sucedido si el sistema se hubiera caído tuvieron ustedes en octubre la suerte de que las emergencias de osakidetza todavía

y yo me voy a dirigir al lehendakari al lehendakari que al fin y al cabo es el responsable máximo de la seguridad y de la salud porque esto no compete solo a seguridad de este país

recapacite en cuanto a la política que están siguiendo esto es un capricho que ha tenido un director del departamento de seguridad contra el criterio de cientos de trabajadores y trabajadoras

hacia atrás y cada minuto cada minuto que no funciona el sistema son tres llamadas que se pierden son tres vidas que están en riesgo y no creo que usted

que utilizamos cuando hay una situación de emergencia una situación de gravedad una de la de cada cuatro llamadas efectivamente están relacionadas con la salud pero le he explicado en más de una ocasión y usted lo vuelve a reiterar aquí a pesar de esa explicación una cosa es la gestión de las llamadas en el

centralizada desde dos mil doce y otra cosa es la atención

siguen estando territorializados territorializados los de álava están en álava

allí están las bomberos allí están los servicios de allí están los servicios de ambulancias no ha cambiado absolutamente nada en ese aspecto

un segundo nivel efectivamente es el sadae el servicio de apoyo a emergencias

funcione de coordinar y de activar los servicios y otra cosa bien diferente son los recursos y dónde se localizan esos recursos y esos recursos están cercanos
próximos y en cada uno de los territorios eskerrik asko beltran de heredia andrea gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa

getxo qué buscamos cuidados a una usuaria de la tercera edad con movilidad reducida cognitivamente correcta las tareas serán soporte y preparación de alimentos vigilancia en las actividades básicas de la vida diaria de la usuaria

y tareas del hogar horario domingo de nueve de la noche a sábado nueve de la mañana salario mil

euros netos mensuales pagas extras de verano y navidad ya incluidas

comparte conmigo señora etxebarrieta avanzar en una euskadi más corresponsable e igualitaria es uno de nuestros retos clave de este siglo veintiuno y de este gobierno también

que me hace aclararle mi personal punto de vista frente al feminizado rol de cuidadora apuesto por la corresponsabilidad de la pareja

apuesto por las renuncias compartidas en pareja y el apoyo institucional a la corresponsabilidad como mujer como madre como hija no quiere renunciar a ser cuidadora

profesional soy creo como usted una de las miles de mujeres que hacemos malabarismos para compatibilizar nuestra vida profesional y familiar y lo cierto es que la realidad nos ofrece una nítida imagen en la que son las mujeres las principales responsables de los cuidados

una unas tareas que vuelvo a poner en valor pues son fundamentales

a pesar del avance en la incorporación de las mujeres al mercado laboral aún se nos asigna la responsabilidad exclusiva o al menos mayoritaria del cuidado de las personas

para el gobierno constituye por tanto una prioridad que vascas y vascos puedan conciliar la vida personal familiar y laboral y es una prioridad que lo puedan hacer en igualdad

la reciente modificación del decreto de conciliación con la incorporación de una excedencia remunerada hasta dieciséis semanas para ambos progenitores es un claro ejemplo de ello obstáculos estructurales como la diferencia salarial entre mujeres y hombres provocan también que la elección sobre quién se acoge a los permisos o a las medidas

y debemos avanzar hacia un cambio de paradigma a la hora de hablar de cómo las necesidades de cuidados que precisa una sociedad avanzada como la nuestra tiene que tener ese cambio viene ya recogido como objetivo en el séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres también en el plan operativo de brecha salarial también en el plan de apoyo a las familias y lo estará

en la estrategia de personas cuidadoras nuestro objetivo es tejer una red de apoyo a los cuidados que sea sostenible en términos de continuidad de calidad de vida

desde el inicio de esta legislatura estamos dando pasos en esa dirección

ya les hemos trasladado desde esta tribuna iniciativas que hemos puesto en marcha para la conciliación corresponsable

también en la equiparación de la disponibilidad de ambos progenitores en el cuidado de los hijos y de las hijas les hemos avanzado también que estamos trabajando en una estrategia de personas cuidadoras

como le decía esta estrategia está siendo formulada y diseñada a través de un proceso participativo con las propias personas mayores con las personas cuidadoras y con los profesionales y las profesionales que trabajan en este ámbito y esta estrategia va a contar también con un análisis sobre la cuantificación y el perfil de las personas cuidadoras esta estrategia también aportará un inventario sobre las personas y servicios de apoyo a las personas cuidadoras

que aprobaremos en el dos mil veinte incluirá un análisis internacional sobre las medidas y planes de atención a las personas cuidadoras de toda índole profesionales y no profesionales con la estrategia pretendemos también reconocer la contribución que realizan las personas cuidadoras al bienestar de toda la sociedad

y que cualitativamente es insustituible es sabido que las personas dependientes siempre han mostrado su preferencia a continuar en su entorno habitual con redes de apoyo informales

para la unión europea recomienda también priorizar la atención en los domicilios para que las personas que envejecen puedan seguir viviendo el mayor tiempo posible en su entorno

los programas de apoyo para garantizar las tareas de cuidado de calidad tanto formales como informales consideramos que cuando una persona en situación de fragilidad

o como profesional lo sentimos como privilegio y es un ejercicio de responsabilidad esta

para poder conocer los procesos de evolución de la dependencia y ofrecer una atención adecuada

de formación de programas de respiro que tengan en cuenta los cuidados de larga duración y la repercusión que esto tiene en las personas cuidadoras estamos

de las personas cuidadoras y también estamos trabajando en colaboración con otros agentes en proyectos innovadores en el ámbito de los cuidados ya que consideramos que tenemos un gran reto por delante se ha avanzado muchísimo en la habilitación de las profesionales que se dedican

la consolidación de la experiencia en competencias laborales y la formación para adquirir nuevas y mejores habilidades de cuidados es uno de los objetivos que tenemos marcado para los próximos años y aunque necesitamos reforzar el cuidado profesional e institucional socialmente no podemos permitirnos perder el cuidado no profesional

llamamos a este cuidado primario porque se considera anterior al institucional y en muchos casos es insustituible pero promovemos también el cuidado profesional reforzando los servicios sociales de responsabilidad pública en el ámbito de los cuidados que incluyen también servicios de respiro y apoyo a personas cuidadoras como les indicaba

y el cuidado ha de ser una opción y no comprometer los proyectos de vida de las mujeres debemos responder a una nueva generación de personas cuidadoras

dispuestas a cuidar pero con apoyos sin comprometer su proyecto de vida

y apoyo a personas cuidadoras con información orientación y formación y además tenemos que abordar la situación de las mujeres mayores que llevan años cuidando muchos años cuidando sin un reconocimiento cuidando trescientos sesenta y cinco días veinticuatro horas y ese reconocimiento

y esas mujeres serán contempladas en la estrategia de cuidados que estamos elaborando

tanto para la persona cuidada como para la cuidadora y procurar en esos casos alternativas

tenemos que cuidar por tanto tanto a los cuidadores informales y profesionales las instituciones vascas llevamos ya trabajando en este sentido muchos años y he de reconocer y agradecer a los responsables institucionales

en nuestra sociedad nosotros desde las competencias que el departamento tenemos

está trabajando en un programa específico para las actuales cuidadoras también tenemos proyectos de estudio de voluntariado vinculado también a beti on estamos

con experiencias ya puestas en marcha en fase de pilotaje iniciativas como ok en casa o nuevos proyectos presentados en europa

además en base al acuerdo presupuestario alcanzado trabajaremos en el diseño y puesta en marcha

con el fin de involucrar a toda la sociedad que promueva otra forma de organizar los cuidados desde un punto de vista transformador como ve para seguir avanzando para mejorar

en esta interpelación tenemos mucho trabajo por hacer tenemos muchos objetivos que alcanzar
y entre todos tenemos que ser capaces de lograrlo mila esker eskerrik asko

de asesoramiento y acompañamiento para ayudas a las empresas a favorecer una mayor conciliación a través de atención

acciones como jornadas elaboración y difusión de guías y manuales y fomento de redes de intercambio de experiencias

de nuevo del plan y de la estrategia de personas cuidadoras cosa que no para de venir a mencionar aquí estamos esperando cuándo llegará porque bueno se le olvida también decir a partir de dónde sale esta petición

un certifica de profesionalidad donde los tres módulos son realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra organización manipulación cocinado y conservación

básico manual de prendas de vestir de ropa de hogar y preparación de camas y tres realizar la limpieza de domicilios particulares me parece que es no entender

y cuando estamos diciendo que el cuidado se está quedando en casa no compartimos esa visión en el que

es el mejor cuidado como la mejor política social es la mejor política social y el estado está obligado a dar ese cuidado las personas tienen derecho a cuidar

el plan de igualdad que hizo la directora

el cambio de paradigma podrían analizarlo ahí por ejemplo pareja versus institución yo le estoy hablando de qué es

usted como institución y si seguimos poniendo encima

de cuidar seguiremos ahondando en el problema que le estaba mencionando al principio

eskerrik asko mahaiburu andrea le reitero señora etxebarrieta que estamos trabajando en clave de presente y de futuro

asentando las bases estables para un cambio de paradigma en la organización corresponsable de los cuidados yo no he dicho que el mejor cuidado es el que se hace por amor yo lo que digo es que no quiero sustituir un cuidado profesional o un cuidado

por un cuidado profesional únicamente creo que son perfectamente compatibles y que yo tengo derecho a cuidar y que también tengo derecho a que las instituciones me presten los servicios profesionales que tengan competencia y que tienen que presentar que tienen que prestarme la estrategia de cuidados

por este gobierno dentro de su plan de estrategias que teníamos que presentar con un calendario que se estableció en el que nosotros nos comprometimos a presentarlo en el año dos mil veinte

en aquella pnl y en aquella proposición también preocupada en esta materia

y que nosotros vamos a ir llevando adelante en los plazos que nos hemos comprometido

en la que las necesidades de los cuidados estén atendidas sin que nadie tenga que renunciar a nada ni a sus ingresos ni tampoco a su carrera profesional y que si quiere cuidar lo pueda hacer con las ayudas que las instituciones le podamos dar y creo que el gobierno en este caso está siendo pionero en muchas medidas para

de la vida personal y laboral y eso creo señora etxebarrieta que nos lo tendrá que reconocer

los programas que estamos poniendo en marcha y usted hacía referencia a uno que tenía que ver con la puesta en marcha en diferentes empresas de iniciativas que trabajan empresas en poner en valor y poner también en conocimiento las buenas prácticas que esas empresas están

empezamos con un proyecto piloto de tres empresas que lo ampliamos a treinta empresas que se ha compartido entre las diferentes empresas para que luego sea posible el que el resto de las empresas que tengan esa sensibilidad y que quieran avanzar en esas materias lo puedan hacer y eso lo estamos haciendo señora etxebarrieta

vamos a iniciativas adicionales para poder seguir avanzando en esas las líneas de trabajo y los planes que nosotros hemos diseñado creo que son

muchas iniciativas y muchos planes como pueden ser el plan de apoyo a las familias como es el plan de igualdad como es la estrategia de personas cuidadoras que en breve presentaremos como es la estrategia y el plan operativo de la brecha salarial como es

para acercarnos al permiso de parentalidad de las dieciséis semanas que no solamente están orientadas al cuidado de los menores o de los niños recién nacidos hasta el primer año de edad sino también para las personas

que tengan que quieran acogerse a esas ayudas se les va a discriminar positivamente en ese sentido y si no

las queremos mejorar los proyectos que se están poniendo en marcha

nuevas solicitudes de los permisos de parentalidad y con este nuevo decreto como le decía

se involucren en el cuidado de las personas dependientes y en las tareas de los cuidados

que desde el servicio de teleasistencia estamos trabajando para ayudar a las personas cuidadoras también estamos trabajando en programas como en casa que sirve para garantizar la seguridad y alargar la permanencia de las personas en su domicilio favoreciendo la

que se dedican del cuidado de esas personas nuestro objetivo es impulsar un nuevo modelo de gobernanza basado en la innovación social para el diseño la implementación la evaluación y la monitorización de las políticas en cuidados de larga

de esos proyectos toda esta legislatura hemos estado trabajando de forma participativa en la agenda nagusi

y vamos a cumplir con el calendario presentando esta estrategia que además como le decía en el presupuesto aprobado o en el que se va a aprobar en breve vendrá

el pasado diecinueve de noviembre el grupo llamado trabajadoras no domesticadas visitaron la comisión de trabajo y justicia para presentarnos el trabajo que habían realizado con el respaldo de la fundación mundubat se trata de un proceso de investigación de acción y de participación un proceso

que parte de realidades concretas a las que pretende transformar antes de continuar toca

una comisión de seguimiento y aprovechamos esta ocasión para agradecer públicamente la oportunidad que se nos dio para participar junto con otros agentes sociales en dicha comisión fue un proceso de gran aprendizaje para elkarrekin podemos eskerrik asko tanto a las trabajadoras no domesticadas

plantea dos líneas de acción por un lado revisar y replantear cómo funcionamos como personas y como sociedad un planteamiento que viene siendo central

poner las vidas en el centro fue el lema como usted bien sabe de la última huelga del ocho de marzo y también ha sido un eje importante en las últimas jornadas feministas

en esta línea tuvimos oportunidad de debatir en este pleno a principios de este año

donde realizó una interpelación al lehendakari y también presentó derivada de la misma

más igualitaria y poner la vida las vidas en el centro en aquella ocasión mi compañera decía

quienes han sacado los cuidados de la oscuridad no hay sistema y no hay proyecto de país justo

sin tener en cuenta los cuidados en todas sus dimensiones y el trabajo que recae sobre las espaldas de las mujeres con voluntad política hay que impulsar un debate profundo

abierto y plural y en este debate se debe comprometer a las administraciones a los agentes sociales a los agentes económicos a las empresas al tercer sector y por supuesto hay que revisar lo que se tenga que revisar

al lehendakari qué se iba a hacer para avanzar hacia una organización social más justa más igualitaria y hacia una sociedad en la que todas y todos con el liderazgo de las instituciones nos hagamos responsables del cuidado y la atención de quienes lo necesitan y de aquella iniciativa

y se alcanzó un acuerdo amplio y haciéndonos

a través del acuerdo presupuestario se va a poner en marcha el plan elkarrekin zaintzen dependiendo

va a promover la democratización de los cuidados otra forma de organizar socialmente el cuidado desde un punto de vista transformador y corresponsable entre el estado el mercado

recoge también el contexto del empleo de hogar la necesidad de hacer un análisis del sector

las violencias que se ejercen en el sector las estrategias de resistencia de las mujeres o las condiciones laborales y de seguridad

pero además de hacer una cartografía del sector en euskadi han realizado un trabajo más allá del diagnóstico y plantean un plan de acción un plan integral que quiere visibilizar y reconocer los múltiples elementos que producen y reproducen los contextos las materialidades los abusos de poder y las violencias del empleo de hogar y de los cuidados en la actualidad propuestas diversas a corto medio y largo plazo medidas concretas ante problemas

son uno de los colectivos de trabajadoras que mayores condiciones de precariedad

un colectivo que en euskadi engloba a cerca

en su inmensa mayoría mujeres cuyas condiciones de trabajo además de ser precarias tienen mucha menos protección que el resto de trabajadores a pesar de algunas conquistas que hay que reconocer que han sido obtenidas en la última década a consta de las reivindicaciones y de la lucha constante de las trabajadoras del sector en gran medida las personas encargadas del hogar y de los cuidados mujeres mujeres que por diferentes motivos económicos familiares deciden ingresar en este empleo como estrategia de supervivencia muchas veces personal y familiar y hay que recordar que en términos generales no se trata de personas

es más en muchas ocasiones ni siquiera se perciben como trabajadoras

es un empleo que se vive como algo temporal transitorio circunstancial que no se suele dimensionar asumir y valorar como otros empleos a esto hay que sumarle

sumamente individualizado sin procesos de organización y sindicalización significativos ni convenios colectivos que respalden a las trabajadoras y fomenten la construcción

cabe recordar que en muchos casos las trabajadoras viven en los domicilios en los que se encuentran empleadas y o pasan más tiempo ahí que en sus propias viviendas de esta forma la casa se vuelve un espacio donde resulta difícil poner límites el tiempo y el lugar de trabajo y de no trabajo se difuminan se abusa de estas situaciones particulares de necesidad y emergencia que a la vez van profundizando

de desarrollo de la propia identidad de las opiniones y de los criterios propios para nuestro grupo parlamentario

de las trabajadoras y en particular las de las mujeres que desempeñan su labor como trabajadoras de hogar es una prioridad en primer lugar porque entendemos que es indispensable el reparto de los cuidados y de los empleos y en segundo lugar

se trata de trabajadoras asalariadas contratadas y como tal deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadoras y trabajadores independientemente

de que estos trabajos pertenezcan a la parte reproductiva o a la parte productiva del sistema son trabajadoras en definitiva y trabajan por lo tanto

que el conjunto de trabajadoras y trabajadores y como ve señora consejera se trata de un sector complejo con vulneraciones destacables que combinan jornadas laborales abusivas

exigencias en clave de deberes que no siempre se compensan con el reconocimiento de los derechos laborales para estas trabajadoras entendemos como ya hemos manifestado en multitud

que la invisibilización y la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados responde a un modelo sociolaboral que no se ajusta al que defendemos desde elkarrekin podemos

es el fruto de un innatismo biológico sino el resultado de la construcción social de las diferencias de género que convierte a las mujeres en sujetos femeninos orientados fundamentalmente hacia el trabajo de la reproducción y a los hombres en sujetos masculinos centrados básicamente en el trabajo de producción

encorseta en estereotipos diferenciados y posibilidades de vida de ambos géneros posicionando a las mujeres en la situación

se consigue que esas diferencias se conviertan en desigualdades y que además

permanezcan invisibles el trabajo reproductivo merece ser valorado y cuantificado el trabajo reproductivo debe ser asumido por el conjunto de la sociedad y no solo en exclusiva por la mayoría de mujeres y ante esta situación señora artolazabal

las medidas concretas que se van a impulsar desde su departamento para mejorar la situación de las trabajadoras del hogar en el ámbito del empleo y las políticas sociales porque señora artolazabal hay mucho margen de mejora y nos podemos detener en las consecuencias de no llevar a cabo estas medidas en los pasos

y de nuestros hijos en definitiva se hacen cargo de las tareas de los cuidados

y lo están pasando mal es un trabajo penoso porque se juegan la salud y qué tienen a cambio muchas veces maltrato bajos salarios y un futuro absolutamente incierto y qué se encuentran de la noche a la mañana que muchas veces

son despedidas no tienen derecho a paro y lanbide les corta

y cuál es su día a día pues que la palabra del empleador siempre prevalece sobre sus voces y por no poder muchas veces no tienen acceso a la inspección de trabajo para las vulneraciones de derechos a las que son sometidas y eso

un problema que en un cien por ciento no podemos resolver desde euskadi con nuestras competencias y con nuestra realidad pero es un problema que tenemos la obligación de abordar para instar

también impulsando determinadas políticas desde su departamento

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea señora garcía en mi anterior respuesta he tratado de poner en valor el trabajo de los cuidados creo que he sido muy clara

para mejorar la situación de un colectivo que para nosotros también es preocupante en las condiciones en las que bueno tienen que desempeñar en ocasiones su trabajo verdad también reconozco que es un colectivo muy feminizado y formado en su mayoría por mujeres migrantes que también

orientado su trabajo al cuidado de las personas que más queremos permítame una pequeña digresión sobre el lenguaje digresión

y muchas veces internas como usted bien dice y fíjese que cuando utilizamos el nombre

para poner en comparación o cuando décimos que los hombres realizan la misma labor ya no utilizamos el término de

parece que queda mejor verdad trabajadoras de hogar y asistentes personales

en realidad su labor es la misma yo sí que quiero aprovechar esta oportunidad que me da para resaltar la contribución a nuestra sociedad de estas personas yo comparto con usted que todos los trabajadores tenemos que tener los mismos derechos y los trabajadores las trabajadoras del hogar nos permiten a muchas mujeres y a muchos hombres poder conciliar y poder llevar adelante nuestros proyectos de vida y no las tenemos que

dejamos cada día las personas que más queremos a nuestros hijos a los niños y a las niñas a nuestras personas mayores y a las personas dependientes y seguir viviendo en nuestro entorno más próximo es siempre clave para el bienestar de todas las personas seguir en nuestras casas solo es posible gracias a la labor en muchas ocasiones de estas trabajadoras

universitario de estudios de género de la universidad carlos tercero realizaron un estudio sobre este colectivo este informe apunta que la ratificación del convenio ciento ochenta y nueve de la organización internacional del trabajo traería importantes cambios normativos y esta ratificación como usted bien sabe y lo ha reconocido no es competencia del gobierno vasco

se tengan que solucionar pero yo creo que el próximo gobierno a nivel estatal tendrá un objetivo claro en materializar las mejoras que este colectivo de mujeres trabajadoras que se encuentra en una situación a veces precaria tengan que modificarse las leyes que sean convenientes

para poder mejorar su situación facilitar la cotización del empleo doméstico

total de un sector que mantiene un crecimiento constante en términos de empleo es verdad

en el hogar cada vez son más pero sin embargo este informe constata

de hogar registradas en la seguridad social cada vez disminuye más

pero no estamos aseguradas estamos favoreciendo o se está

sí que es un problema un problema que tenemos que atajar porque tiene una serie de connotaciones muy importantes para ellas y para la economía también

de nosotros y de nosotras de acabar con esta economía sumergida y ahí creo que las instituciones tenemos una obligación tenemos que hacer ese seguimiento tenemos que hacer esas inspecciones pero también los ciudadanos y ciudadanas que contratamos a esas personas tenemos que contratarles con las condiciones en base a sus derechos

condiciones laborales en relación a su salario en relación a sus permisos que sean dignas y que sean lo que realmente se merecen y ahí nosotros tenemos mucho que

de hogar de la seguridad social y eso también es una parte importante de las personas que se dedican a los cuidados las mujeres

tendríamos un problema muy serio en relación a la atención que tenemos que hacer y a la atención que nuestras personas más queridas tienen que tener

es lo que usted ha trasladado en esa reunión en ese grupo de trabajo que se realizó etxebarrieta andreari erantzun diodan bezala

en un estudio de la unión europea que hemos mencionado en la anterior interpelación que le hacía y le respondía a la señora etxebarrieta se recomienda a los estados prestar especial atención al papel y a la situación de las trabajadoras de hogar migrantes especialmente en su condición calificaciones y condiciones de trabajo yo en interpelaciones que ya se le han formulado a la consejera san josé les ha trasladado los avances que desde el departamento

en el ámbito de las políticas sociales estas trabajadoras en este momento ya pueden acogerse a las ayudas prestaciones o excedencias previstas en el decreto de conciliación vigente desde este mes de noviembre anteriormente eso no era posible las mujeres que trabajaban en el ámbito del hogar las trabajadoras del hogar no tenían la posibilidad de acogerse a estas ayudas

nos compete y hemos regulado también en ese mismo decreto se recoge que en la modalidad de ayudas a la conciliación para contratación de personal se subvencionará la contratación de personas dadas de alta en el régimen especial para empleadas de hogar

trabajadora del hogar se coge una excedencia o tiene se coge algún tipo de ayuda

perdón disfruta de ese derecho

que por ella tiene que hacer el empleador que la tenga contratada el objetivo por tanto es claro promover la contratación y evitar la economía sumergida eso son dos retos importantes que creemos que con este decreto vamos a por lo menos evitar y si fuera posible eliminar en estos años hemos procedido también a la regulación profesional de las personas trabajadoras que atienden a dependientes porque como usted bien sabe

esas ayudas las personas que solicitan a las instituciones en este caso suelen ser en su mayoría las diputaciones forales

personas que se dedican a estos cuidados que no tienen esa formación la puedan acreditar

profesionales en los cuidados contará con esa acreditación laboral y esto lo estamos haciendo en colaboración con lanbide estableciendo diversos programas de formación en el último conteo se habían concedido ya más de cuatro mil setecientos

a aquellas personas que trabajan en los cuidados todo ello hace un total de más de diez mil doscientos habilitaciones como sabe desde madrid se tardó en desarrollar esta cuestión

que se ampliase ese plazo para las acreditaciones y esperamos que para el año dos mil veintidós todas las personas que se dedican a este cuidado cuenten con la formación suficiente y acrediten esa formación

a que esas mujeres tengan ese proceso de cualificación antes del treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós y para eso estamos realizando esos programas de

desde el año dos mil dieciocho nuestro departamento también ha colaborado con el instituto vasco de conocimiento de la formación profesional hemos preparado y planificado convocatorias en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias para

también se ha facilitado a las mujeres que realizan esas labores de atención con contrato en labores domésticas la opción de acceder a los procesos de habilitación porque usted ya sabe que a veces esos horarios complejos les impedían el poder acceder a los cursos de formación

para que puedan acreditar esa formación que les exigimos

de auxiliar de ayuda a domicilio porque usted sabe que muchas de estas mujeres están trabajando no tienen

mediante la forma de acreditación vía contrato es posible que los módulos que tengan que hacer sean inferiores a la formación

pero como usted ha dicho tenemos un acuerdo presupuestario y seguiremos avanzando

eskerrik asko mahaiburu andrea señora artolazabal usted sabe que más allá de las cuestiones cuya competencia

nuestro grupo ya trabaja en el congreso de los diputados al igual que lo ha venido haciendo

en anteriores legislaturas y que compartimos que

al margen que hay también una responsabilidad

hay mucho trabajo que aún se puede hacer y que todavía no está hecho tiene usted que reconocer que ante la falta de respaldos colectivos

de lanbide como oficina de intermediación y colocación del sector es otra carencia importante de las instituciones que trae consecuencias nefastas para las trabajadoras al dejarlas expuestas

privadas de colocación y paralelo a esto y en contraposición lanbide sí que se muestra bastante eficiente en el recrudecimiento de requisitos en la penalización y el hostigamiento constante

cuando gestiona controla otros recursos todo esto es una evidencia de que las instituciones públicas tienen todavía sesgos de género

bien de lanbide bien de la seguridad social no se ha recibido toda la información ni el asesoramiento necesario a veces la información se proporciona de manera incompleta

de interpretación por lo tanto como le digo señora artolazabal hay medidas concretas que se pueden abordar e impulsar y que van más allá de las campañas

dirigidas a la sociedad en conjunto y que van más allá que

y del debate que podemos tener en un marco general sobre el sistema de cuidados en euskadi

por ejemplo de campañas informativas sobre los derechos y las obligaciones laborales dirigida tanto a las personas emprendedoras y trabajadoras como a las personas trabajadoras del hogar y de los cuidados

que habría que dar sobre la normativa vigente y sobre el marco legal y más actualizándolo para las personas funcionarias y las que tienen atención al público dentro de la administración pública le estaba hablado también de que se distribuyera una guía informativa sobre los derechos y obligaciones laborales

como a la parte emprendedora para prevenir con información las vulneraciones y los incumplimientos de derechos y los deberes vigentes y le hablaba también de velar por el cumplimiento

con acciones de seguimiento de control y de sanción controlando sancionando y

hay un incumplimiento o una vulneración de los deberes y los derechos dentro del marco de esta relación laboral tanto

como del oficio y comprobar por ejemplo las condiciones y alojamiento y manutención el cumplimiento

en la entrevista laboral el cumplimiento de los tiempos de descanso estipulados

y el salario percibido o la no transferencia de los costes

al legalmente establecido a la parte trabajadora o el propio cumplimiento del derecho al pago con nómina además de

las condiciones reales de trabajo es muy importante señora artolazabal exigir a lanbide el control y el registro de los contratos escritos

y su ajuste a las condiciones planteadas tendría que ser para nuestro grupo parlamentario un requisito para proceder a dar de alta en la seguridad social una vez que se presentaran los contratos lanbide tendría que citar a la trabajadora y hacerle una entrevista para ver si lo que figura por escrito

además se debería supervisar y verificar con la parte trabajadora las altas y las bajas cuando se finaliza una relación laboral en definitiva unificar

y de gestión de la información de la documentación diseñando implementando un protocolo de funcionamiento en la administración pública

queremos y seguiremos trabajando porque esto se lleve adelante sin demora le hemos preguntado por medidas concretas le estamos respondiendo con medidas concretas y nos parece estupendo

y un discurso sobre la política general de cuidados pero le pido por favor que me hable de medidas concretas eskerrik asko

que el sector de las trabajadoras del hogar es un sector claramente feminizado y usted me dice que le diga medidas concretas yo creo que le he dicho medidas concretas en relación

las mujeres que son trabajadoras empleadas del hogar por primera vez tienen la posibilidad de tener esos derechos para poder llevar adelante

que en este momento no podrían ser siempre y cuando se contrate alguien en su lugar que esté dado

yo creo que no sé si se confunde a la hora de hacerme la interpelación a mí pero yo de todo lo que usted ha comentado y no es escurrir el bulto creo que cuando habla de derechos y obligaciones laborales

cuando también habla del control y la sanción que por supuesto yo creo que es obligado que se lleve adelante esa inspección le corresponde también al departamento de trabajo

llevando adelante esas inspecciones que están poniendo encima de la mesa situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores y creo sinceramente compartiendo su preocupación la consejera san josé tiene muchas más herramientas en esa materia que yo para poder llevar adelante tanto el control y el seguimiento de esos contratos derechos y obligaciones nosotros sí que compartimos y desde luego creemos que es nuestra obligación el llevar adelante esa formación y sensibilización

en la materia de los cuidados y para ello la estrategia y el plan operativo para reducir la brecha salarial recoge impulsa numerosas iniciativas que pueden resultar claves para la organización de la sociedad vasca del futuro debemos seguir apostando como le decía en mi anterior

parte de eso pasa por la formación que resulta fundamental para poder empoderarlas que tengan esa formación que pueda permitirles obtener unas mejores condiciones laborales y para ello vamos a seguir trabajando en esa línea líneas de trabajo que hacen que estas mujeres puedan mejorar su situación laboral y también estamos impulsando iniciativas piloto de la mano del centro nazaret de la fundación matia en esta materia

de referencia en el marco de la atención centrada en las personas que esperemos que les favorezca para seguir avanzando en su itinerario laboral

de lanbide lanbide lo que va a hacer si las personas se acercan a lanbide a poder solicitarles mujeres

es establecer una serie de personas que cumple con los requisitos que el empleador quiere hacer pero es que ese perfil de personas ese empleador no se acerca lanbide generalmente las mujeres empleadas de hogar no son contratadas

en el boca a boca a la hora de poder establecer esos contratos

eso sí la persona que se acerca a lanbide desde luego va a contar con el asesoramiento la orientación

la selección de la persona que quiere que esté en su hogar no comparto con usted y desde luego

es cierto que se produzca un hostigamiento constante en lanbide a las personas que trabajan y que se acercan a lanbide eso no es cierto eso más bien es falso desde lanbide lo que se hace es un trabajo con profesionalidad en base a la legislación y a la legalidad vigente con el objetivo de cumplir la misma

las herramientas que tenemos de cara a que aquella persona independientemente de su condición tenga esos elementos que les permita seguir avanzando yo le he escuchado

mucho interés sobre lo que tenemos que seguir haciendo y

trabajando a nivel interdepartamental y también con ustedes para poder mejorar las condiciones que estas mujeres tienen pero sí que quiero reconocer

que realizan esas funciones y esas tareas darles la importancia que se merecen

nosotros individualmente tenemos un trabajo muy importante eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

consejera desde que anunció el acuerdo en materia de rgi con el grupo podemos se provocó la inmediata reacción del partido popular fue el señor damborenea quien

a la rgi no había nada que favoreciera a la gente que vive en la calle

a lo que añadía a continuación que será más rentable cobrar la rgi que ir a trabajar un paréntesis en el razonamiento de esta pregunta porque voy a aclarar una vez más que

o que pretenden instalarnos en una guerra de los penúltimos contra los últimos cierro paréntesis

por encima de esa dialéctica erística utilizada por el señor damborenea la reacción hiperventilada del partido popular se centraba en tres elementos la cuantía pactada

y la tercera el presupuesto destinado a la rgi bien a nosotros y nosotras

y por qué no las comprendemos pues miren este grupo antes de forjarse una opinión

en el dos mil diecisiete y en el dos mil dieciocho y en esta ocasión ha analizado también el acuerdo que alcanzaron con el grupo podemos y qué podemos concluir

se establece por ley y que las disposiciones adicionales de los diferentes actos presupuestarios desde el dos mil trece

lo que podemos ver es cómo con los acuerdos con el partido popular la cuantía se reducía entre noventa y dos y ciento diez euros y

se reducirá en doscientos treinta euros no sale mucho mejor parados los pensionistas de ese acuerdo

en este caso se reducirá el complemento de pensiones en doscientos cincuenta y cuatro euros al mes también se preocupaba el partido popular por la distancia entre la rgi y el smi pues vamos a ver qué pasa con esa distancia

era entre un veintitrés y un veinticinco por ciento la distancia pactada con podemos se incrementará hasta el treinta y cuatro por ciento también se preocupaba el partido popular por el presupuesto destinado para la rgi pues bien en el acuerdo

a la renta de garantía de ingresos y en cambio el próximo año se destinarán trescientos setenta millónes de euros es decir si antes destinaban el tres coma seis por ciento del presupuesto a la renta de garantía de ingresos ahora destinarán solo el tres coma uno por ciento

podemos concluir uno que la cuantía

del veinticinco por ciento con el grupo podemos que la distancia

y que el presupuesto destinado a la rgi se reduce en treinta y dos millónes de euros por lo tanto

no están justificadas que desde la posición ideológica del partido popular

con un acuerdo que reduce las cuantías que aumenta la distancia

señor rodriguez yo creo que la pregunta se la debía haber formulado al señor damborenea porque

que acabo de regresar de una conferencia en canarias que ante el interés del gobierno de canarias por conocer las bondades y el sistema de rgi de euskadi

todas las personas que estaban allí mostraron su admiración y su interés por nuestro sistema entiendo que usted

yo creo que estas palabras fueron desacertadas que no comparto que se viertan sobre todas las personas beneficiarias de nuestro sistema de protección esos bulos pero tampoco lo que usted ha dicho es verdad

la cuantía que las personas que perciban la rgi en el año dos mil veinte sea superior a la del año dos mil diecinueve y además el año pasado ustedes tuvieron la posibilidad de acordar con nosotros

no se llegó a concluir hablábamos hasta de siete por ciento y ustedes

de lo que dicen no solamente echar a los demás una serie de cuestiones no comparto como le digo que se digan esos bulos y no estoy de acuerdo

la mayoría de las personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos salvo los pensionistas están trabajando y por tanto su mayor deseo es acceder al mercado laboral y saben que a través del empleo pueden acceder a esos ingresos pero también a la integración de la sociedad

de las subidas anuales porque desde el año dos mil quince

y eso es como consecuencia de que la economía está dando oportunidades incluso a las personas que en una situación más vulnerable se encuentran

el acceso al empleo de estas personas perceptoras y gracias esos estímulos al empleo las personas ocupadas que percibían esas prestaciones han podido abandonar esa situación

las personas en este momento están trabajando y no es necesario dotar de más presupuesto porque además como usted bien sabe es una partida ampliable porque es un derecho subjetivo

yo sinceramente me hace una pregunta en relación a unas declaraciones vertidas por el señor damborenea no las comparto las rechazo y eso es lo que yo

y creo que es en el que tenemos que seguir avanzando para seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país

lehendakari andrea le voy a facilitar la respuesta a la pregunta dígame si es cierto o no es cierto

que el que va a destinar el acuerdo presupuestario con podemos segundo dígame si es cierto o no es cierto

en relación a la pregunta que usted me hacía quiero

no es en esta situación la cuantía que pueda recibir una persona

lo que me preocupa a mí realmente es que se traslade la idea de que disponer de un sistema de protección perjudica al conjunto de la sociedad y esto es al final lo que podemos estar

en relación a una serie de comentarios que se están trasladando por diferentes fuerzas políticas

el acuerdo presupuestario va a venir a beneficiar a muchas personas y que creo que van a estar mejor protegidas

han sido declaraciones literales hechas por ti sin más

que han sido literales

punto no afecta ni a tu conducta nada de nada no

consejera consejeros señorías bien señora murga

semana para preguntarle sobre cuestiones que tienen que ver con la salud fundamentalmente pero esas cuestiones que tienen que ver con la salud ligadas al clima

al medioambiente cuestiones desde luego íntimamente relacionadas y que

seguir trabajando en ellas hay muchas luces de alarma muchas situaciones complicadas hay perspectiva de nuevos planes de nuevas actuaciones

las posiciones de los estados participantes de los mandatarios en lo que

en lo que tiene que ser una política de estrategia también de la salud y de medio ambiente

y además esas íntimas conexiones con las políticas sanitarias de salud pública

una vez más y trabajar y por lo menos reflexionar conjuntamente a los distintos niveles gubernamentales con competencias en ambas actuaciones estratégicas que tienen que ser coordinadas

clima medio ambiente en relación con otras muchas cuestiones además a las que afecta las políticas de salud pública y las medioambientales

industriales las energéticas las alimentarias las de explotación agrícola

reflexión y un esfuerzo conjunto y de facto además de los poderes públicos en cada ámbito de hemos visto se ha anunciado y se ha visto en la prensa

el anuncio de que los próximos meses el ministerio presentará lo que ha denominado un plan nacional de salud y medio ambiente el ministerio de sanidad es decir que no es el ministerio de medio ambiente parece que lo lidera y

el ministerio de sanidad está claro que es algo importante y por lo que hay que interesarse

y que nosotros queremos hacerlo está claro también hay que reconocerlo que ha habido

de salud pública o planes anteriores tengo que reconocer

consejera en aquel momento de medio ambiente el señor inclán consejero de salud presentaron también con salud y medio ambiente dos mil siete

hilando a partir de ese documento y que forman parte también de los documentos de salud pública o de los documentos de ordinarios de actuación de la administración en relación con la

pero hay que describir también nuevos fenómenos cuestiones que van incidiendo en el día a día de las políticas de salud ligadas

incluidas en esa materia en ese sector hay descripción de esos factores ambientales que influyen en la salud pública en la salud humana su modificación o la alteración

y la modificación de esos factores ambientales supone inequívocamente una alteración y una modificación de los factores de salud humana está claro y en ese sentido y en ese plan que parece que se va a

de una manera más intensa o más se nos habla de la contaminación por supuesto y además en relación con compromisos que hay que atajar

han adquirido en el marco de la oms y sugerencias y

organización mundial de la salud en relación con lógicamente de lo que ya se ha hablado también pero hay que ser hablando como elemento fundamental de calidad del aire de calidad del agua está bien claro que

los productos químicos que nos rodean por todos los lados los disruptores endocrinos esas sustancias contaminantes que cada día son más eso se aprecia y eso se dice por los organismos especializados

una herramienta importantísima en salud pública la radioactividad ambiental también elemento

radiaciones ionizantes la radiación ultravioleta el ruido

se modifican varían mucho más se desplazan mucho más que en otras épocas

una serie de cuestiones que tienen que ver con esa vinculación de lo que es la calidad de nuestro clima la calidad medioambiental con la salud

en cualquier caso en particular como decía antes y por eso también nos interesa su opinión la ministra en el marco

dijo que en los próximos meses habría un plan para reducir determinados impactos del cambio climático en la salud y eso nos interesa saber cómo vincula eso también

en este tema tenemos que actuar de una manera conjunta y además la propia ministra de sanidad

que ese enfoque que aboga por incluir a la salud en todas esas políticas

que ver con las de medio ambiente y cambio climático

regionales aparte de las personas expertas los gobiernos de las comunidades autónomas como implicadas también en la elaboración de ese plan que describirá esos factores ambientales

y que establecerá esos objetivos de intervención en relación con el impacto sobre la salud

todas esas cuestiones que tienen que ver con lo que nos afecta

para concluir esta primera intervención es decir tenemos que ver como elemento también que llama la atención

estudio no que la aema la agencia europea del medio ambiente ha realizado no yo he visto que está publicado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve

dos mil veinte sobre la situación del medio ambiente en europa dos mil veinte es una cosa de llamativa porque la esa agencia europea del medio ambiente ha dicho

en cualquier caso parece que no es una pero el asunto el asunto es que también

y sobre todo se refiere a la salud humana siguen siendo preocupantes él dice claramente ese informe de aema el estado del medio ambiente ha empeorado las perspectivas son variadas

general en la salud humana y la alimentación humana o sea son elementos fundamentales y en ese sentido

con la vista puesta en el corto plazo pero también en el futuro

estratégicos el departamento algo tendrá que decirnos en relación con lo que son sus propias iniciativas en relación con estos planes en relación con

y el cambio climático y el medio ambiente y también con su participación en el plan

presidente andrea legebiltzarkideok barrio jauna comparto con usted señor barrio

interinstitucional de las políticas de salud y estamos de acuerdo en la necesidad de reflexionar y compartir así como de compartir

va a provocar y provoca ya en nuestra salud la salud de las personas y las poblaciones dependen de diversos factores entre los que se encuentran

estilos de vida medio ambiente físico económico social la posición de las personas en la escala social y el acceso a los recursos y servicios básicos

la educación y la atención sanitaria de ahí que intervenciones realizadas desde fuera del ámbito sanitario también ejercen un papel determinante en la salud de la comunidad y que las actuaciones dirigidas a estos niveles sean más efectivas a la hora de conseguir mejoras

esa es la razón de que este gobierno venga aplicando en todas sus actuaciones el enfoque de salud en todas las políticas que es como sabe la piedra angular de nuestro plan de salud dos mil trece dos mil veinte

hori da osasuna bere politika guztietara eraman precisamente por ello me gustaría precisar que sería más exacto hablar

en su interpelación aunque ha hecho un reconocimiento de lo que llevamos andado y cómo avanzamos sino de las políticas que ya

desde hace años en euskadi con el impulso del gobierno vasco y la implicación del resto de instituciones del país y en las que por supuesto seguiremos

como digo todo ello dentro del contexto del plan de salud que se conecta con otros marcos referenciales entre ellos el cuarto programa marco ambiente

en el que se inscribe el proyecto denominado territorio saludable donde participa el departamento de salud junto al de medio ambiente la agencia

y en cuyo marco se desarrollan actuaciones ligadas a la planificación territorial el aire

de la salud también la estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible dos mil dos dos mil veinte

aztertuta vamos a analizar por apartados en lo que respecta a calidad del aire y salud la situación actual es de cumplimiento casi total de los niveles de calidad de aire los índices de contaminación los registra diariamente la red de calidad del aire de euskadi

a los parámetros definidos por la agencia europea de medio ambiente a pesar de ello se está trabajando por supuesto con el resto de departamentos e instituciones implicadas para ir más allá

y reducir el impacto de la contaminación del aire sobre la salud de la población como saben periódicamente se publican los mapas de calidad del aire por municipio y contamos también con informes anuales sobre la calidad del aire en euskadi en lo que concierne al agua y salud el programa de vigilancia y control de las aguas de consumo público del departamento de salud

es una vigilancia sanitaria para asegurar el control de los riesgos para la salud de los cambios en el agua de consumo como balance del trabajo realizado en los últimos treinta años

de la calidad del agua distribuida así como un avance

de la vigilancia de este agua de consumo contamos con un sistema de información flexible y transparente ekuis a través del cual la ciudadanía vasca puede conocer la calidad del agua y los resultados de los análisis realizados en todos los sistemas de abastecimiento de euskadi en sintonía

y del consejo relativo al acceso al público a la información medioambiental lógicamente la calidad del agua no está exenta de nuevas amenazas para la salud

ha resaltado de forma que nuevos contaminantes no solo químicos sino como también ha mencionado la presencia de nuevas especies

parásitos y otras requieren la atención sanitaria presente y del futuro esto constituye un reto en el que cada vez es más necesario

que intervienen en los abastecimientos y en la gestión del ciclo del agua porque en esto es importante que participe también todos los organismos

departamento de salud entidades locales empresas unidades de control vigilancia y laboratorios

entre el departamento de salud con la agencia vasca del agua ura

de protección de calidad del agua de consumo público en virtud de este convenio se están llevando a cabo actuaciones para que el agua llegue al grifo de las y los consumidores

desde el origen es decir desde las captaciones del agua para este fin también lleva años en marcha el plan de actuación para el control de la legionelosis

y reducir la incidencia de casos en euskadi de esta enfermedad se hace control y seguimiento de las instalaciones de riego para lo cual se cuenta con la colaboración de osalan en la que respecto al ámbito laboral

las actuaciones derivadas de este plan han propiciado importantes reformas estructurales en las instalaciones y en el establecimiento en ellas

que a su vez se han traducido en un aumento de la seguridad asimismo destacaría las actuaciones en zonas de baño

tanto en lo que se refiere a la calidad del agua como al entorno que rodea a las mismas en dos mil diecinueve

como buena en el dieciocho y como aceptable en el dos por ciento no existió ninguna calificación como insuficiente en cuanto a suelos y salud recordemos que la ley cuatro barra dos mil quince de veinticinco de junio

proteger el suelo de euskadi previniendo la alteración de sus características químicas derivadas de la acción humana sobre el control de productos químicos euskadi participa dentro de la red estatal de inspección y control de productos químicos y en proyectos de europeos de vigilancia y control

por citar algunos ejemplos destacaría nuestra participación en proyectos europeos para estudiar los efectos de la contaminación atmosférica en la salud también

cuyo objetivo es analizar los efectos de los contaminantes ambientales en las primeras fases de la vida es un gran reto el cambio climático

al cumplimiento del protocolo de kioto euskadi se ha unido en dos mil diecinueve al proyecto life urban klima un proyecto ambicioso

y en el que como sabrán participan varios departamentos del gobierno vasco entre ellos el de salud tres diputaciones siete municipios cinco centros tecnológicos

dentro del marco del plan oncológico trabajamos también para reducir las radiaciones diagnósticas y terapéuticas y el historial dosimétrico mejorarlo para evitar los efectos de las radiaciones ionizantes en la salud y

y la prevención del cáncer dérmico podría extenderme más pero dado que el tiempo es limitado remarcar para concluir en esta primera intervención que agradezco su reconocimiento a nuestras actuaciones y que el ministerio de sanidad

ahora presentar un plan nacional de salud y medio ambiente como siempre estaremos dispuestos a colaborar pero como he intentado explicar en intervención euskadi

desde hace años y de una manera coordinada eskerrik asko eskerrik asko murga andrea barrio jauna zurea da hitza

gracias presidenta sí pues gracias señora murga por sus explicaciones efectivamente pues ya conocíamos

poco de visión de futuro no hacia dónde hay que caminar ya se han hecho esfuerzos desde luego pero

factores que siguen incidiendo y que se siguen sobreponiendo día a día a la salud

de cuestiones ajenas estrictamente a las cuestiones de salud a esos factores

resumen de otros tipos de factores esos de carácter social de carácter biológico de carácter

que hemos visto que algunas de ellas es decir tienen que algunas

se han ido agravando en algunas y algunos factores de esos se han agravado no eso es lo que por eso

estudio que la agencia europea del medio ambiente acaba de hacer en relación con el estado del medio ambiente que ha empeorado

variadas y por eso mismo la clave de nuestra interpelación es el impulso a las actuaciones coordinadas y conjuntas

está claro que no somos una isla lo local es importantísimo y efectivamente usted nos ha hablado de esa

y otras instituciones vascas pero nosotros consideramos muy importante la actuación coordinada en el marco de ámbitos tan importantes como

y por eso me refería yo a esas claves que el informe de la agencia europea de medio ambiente hacía no en relación con la salud

con la alimentación en estas cuestiones que tienen que ver con el empeoramiento del medio ambiente eso es una cuestión fundamental ese ámbito

yo creo que es una de las referencias interesantes que podemos sacar hoy de la cumbre

como otras que se han celebrado que se ha celebrado en madrid en relación con las necesidades de unir esfuerzos las necesidades de unir esfuerzos parece además que el conjunto de las administraciones por lo que se nos dice todos los días hay apelaciones permanentemente a la clase política a los políticos a tomar decisiones a avanzar

en manos de la política de los gobiernos parece que el conjunto de las administraciones tiene que dar un paso más allá un paso más allá al reconocimiento que se han hecho cosas en unos sitios

dar un paso más allá en la actuación conjunta reconociendo los esfuerzos también y en esas estrategias también

aquí como en tantas cosas el derecho a decidir pertenece a una comunidad amplia a europa a españa

derecho global del mundo o sea en ese sentido hay que

el plan que anuncia el ministerio de sanidad liderando un plan de salud y medio ambiente

que ha contado con los gobiernos regionales y sí que nos gustaría señora consejera

el ministerio de sanidad es socialista pero quiero decir

de sanidad ha dicho que cuenta con los gobiernos regionales

la implementación de ese plan que vuelvo a decir es un plan supuestamente ambicioso y que va a responder a esos nuevos retos de los que usted y yo hemos hablado de factores que inciden en el medio ambiente y de paso en la salud o sea cómo va a participar cómo está participando

cómo se coordinan esas actuaciones en definitiva la conclusión actuación coordinada es el elemento fundamental para luchar todos desde el ámbito más pequeño que es el ciudadano hasta el más amplio que son los gobiernos a todos los niveles cómo se está actuando
en esa labor muchas gracias eskerrik asko barrio jauna murga andrea zurea da hitza

en los resultados en salud y en el cuidado del medio ambiente y por supuesto de la alimentación y por ello las puertas de este departamento han estado

a las aportaciones innovación el trabajo en común y a

en la que podamos colaborar siempre que esto como en este caso suponga un bien común para la ciudadanía de euskadi siempre hemos colaborado con los planes participando las personas del departamento conjuntamente en todo aquello que se nos solicita de hecho esta muestra de nuestra capacidad de trabajo

es que todas nuestras políticas se conocen están publicadas como puede ser nuestra salud en todas las políticas y nuestro plan de salud

que la acción del gobierno vasco es consecuente con la consideración de que la salud de todas las personas está influenciada directamente por el entorno

cómo vivimos respiramos trabajamos comemos nos movemos o disfrutamos del ocio está condicionando nuestra vida y nuestra salud y las decisiones que tomamos y la colaboración entre todos puede hacer que estos determinantes cambien

porque seguro que usted y yo coincidimos en que algunos de nuestros mayores desafíos en materia sanitaria en los que están los riesgos medioambientales

son muy complejos y suelen estar interrelacionados precisamente por efectos de estos determinantes múltiples

desde luego en euskadi venimos apostando durante años por un enfoque intersectorial de las políticas públicas y de la coordinación en todo momento con el resto del estado

para lo que se nos llama y tenga beneficio para la población de euskadi en el que se tiene siempre en cuenta de forma sistemática

son los efectos sobre la población y la repercusión sanitaria en las decisiones en los ámbitos en que se vayan a tomar y siempre promovemos sinergias entre todos los sectores porque hace un tiempo que entendimos

ubera andrea comenzaré haciendo un breve repaso del contexto del servicio por el que se provee aquello necesario para preparar las dietas de los pacientes ingresados en la osi araba que quiero recordar

ambos en la osi araba desde el año dos mil dieciséis esta previsión se realiza a través de un contrato de proveedor único que engloba alimentos

y los fungibles necesarios para proporcionar las dietas de la osi araba preparadas en dos cocinas que se encuentran en cada uno de estos hospitales

a cargo de esta licitación se preparan en las cocinas del hospital de santiago las dietas del hospital psiquiátrico de araba también en este mismo contrato además se incorpora la explotación de las cafeterías comedor igualmente en dos sedes estamos hablando de aproximadamente

de dieta que incluyen desayuno comida merienda y cenas anuales esta cifra

alimentarios en txagorritxu y de ciento cuarenta mil aproximadamente en santiago

el hecho de que los pacientes en los tres hospitales tengan diferentes características sin duda

son mayores porque los pacientes que allí se atienden requieren de otro tipo de alimentación por ejemplo

hospital psiquiátrico se ofrecen un mayor número de dietas terapéuticas dirigidas a pacientes crónicos con estancias prolongadas sin enfermedad aguda en concreto el setenta y cinco por ciento de las dietas son terapéuticas en estos centros en torno a un treinta por ciento de este tipo de dietas

lo que significa que la materia prima necesaria es más costosa que si se trataran de dietas basales

a un hospital rehabilitador monográfico ello ha supuesto que las y los pacientes sean más jóvenes y que por su específica tipología

en la condimentación con el consiguiente encarecimiento que ello ha supuesto esta petición fue refrendada por el jefe de medicina interna

y supervisada por dietistas consecuentemente

también influye en esas cifras más costosas

por lo tanto el tipo de pacientes que atiende cada hospital sí que influye pero de igual modo otros aspectos como contar con diferentes responsables de cocina

etcétera que hace difícilmente comparables aspectos contables de ambos centros aunque pertenezcan a la misma osi y se gestionen por el mismo contrato resaltar por todo ello

único de hostelería es un expediente ciertamente con múltiples particularidades así hasta el año dos mil doce

mediante un expediente de proveedor único mientras que el hospital santiago realizaba su propia gestión de compras a través de diferentes expedientes la pasada legislatura apostamos por una transformación del modelo asistencial pero también de gestión avanzando hacia modelos integrales creando las osi

desde el punto de vista económico se apuesta por unificar concursos y contratos en el año dos mil dieciséis se crea la osi araba con unas peculiaridades específicas ya que gestiona dos sedes hospitalarias en este contexto en el dos mil dieciséis se realiza el expediente de proveedor único de hostelería para la osi araba que incluye la contratación de toda la materia prima consumible y gestión de cafeterías único contrato para gestionar

de ambas cocinas totalmente diferentes es decir este contrato único incluye como usted ha mencionado todos los alimentos para elaborar todas las dietas

para ambas cocinas pero también para tres hospitales y con determinadas referencias pero no por ejemplo su reposición

buscando la unificación de procesos y procedimientos en ambos centros dicho esto el motivo que le llevó

unificado de proveedor único de hostelería fue la integración de ambos hospitales en un único centro y por consiguiente y en concreto en el caso que nos ocupa

para proveer el conjunto de la hostelería lo que conlleva un itinerario de confluencia de gobernanza y de gestión en el que sigue avanzando la osi araba

por expedientes de proveedor único de hostelería para ambas cocinas

ya que debe garantizar la dieta adecuada para diferentes perfiles de profesionales el material para dar servicio a un hospital fuera del edificio como es el caso del hospital psiquiátrico que se sirve desde santiago esta afirmación se materializa en el hecho de que durante los últimos años

adjudicatarias de este contrato se da el caso de que se ha reducido la cifra de las empresas que se presentan a las licitaciones y varias de estas empresas han manifestado la dificultad en cuanto a su ejecución

los datos a los que ha tenido acceso el sindicato lab para acusar a la osi araba de irregularidades son datos que se han publicado en la intranet de la propia osi

en muchos casos apuntes contables pero parciales y sin trazabilidad que deben ser valorados junto a los pliegos de los contratos sus anexos

sin ser completados con estos aspectos pueden dar lugar a conclusiones desviadas así lo ha señalado públicamente la propia osi

porque este sindicato decidió acudir a la fiscalía sin haberse reunido con la osi araba para aclarar cualquier duda que pudiera tener según

el día dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve el sindicato lab y no antes estuvo en contacto con algunos miembros de la dirección de la osi araba

y comunicaron posibles irregularidades se les dio cita para el día siguiente para poder aclarar cualquier duda que tuvieran al respecto sin embargo el diecinueve de noviembre lab excusa su asistencia a dicha reunión aclaratoria por lo que se les vuelve a convocar para el veinte cita nuevamente alegan la imposibilidad de asistir sin embargo sin haber podido esclarecer y contrastar los datos o dudas la osi araba

y que ha enviado a los medios de comunicación una nota de prensa acusándoles de irregularidades estamos ante un expediente complejo y muy particular que unifica diferentes operativas en un único expediente

contables compartidos por servicios de la organización para la gestión

interpretar diferencias entre centros como irregularidades no aclarar posibles dudas y pasar directamente a la denuncia

a priori no parece la mejor forma de apoyar la gestión de un servicio público por nuestra parte conocidos esta denuncia y estos hechos

ha conformado un equipo de trabajo que está verificando las condiciones

la oferta de proveedores y la estructura del servicio de hostelería de la

esta denuncia lo que a día de hoy desconocemos y se dirija a la osi araba no dude de que se colaborará y se remitirá toda la información que se solicite

ubera andrea zurea da hitza no me tome el pelo señora murga

ni que los jóvenes comen más que los mayores no no estamos hablando de suministros de material fungible punto hemen dago kontratazio bat eta pliego bat

santiago txagorritxu psiquiátrico no tiene nada que ver

eta ez nahastu no tiene nada que ver ni con alimentos ni dietas ni que unos comen más otros comen menos no tiene nada que ver ni con el psiquiátrico estamos hablando de suministro de material fungible

somos conscientes de que nos toca gestionar dinero público y la responsabilidad que ello supone y en ello están implicados

diru publikoaren gestio on bat egitea eta egunero saiatzen gara está claro que puede haber diferentes formas de gestionar

y la transparencia por ello y con el objetivo de mejorar día a día la osi araba está implementando nuevas medidas de gestión

en reducir las diferencias operativas entre ambas cocinas para lo que realizaba un seguimiento de la ejecución del contrato en cada sede y así

en los pliegos del expediente durante toda la ejecución del mismo asimismo mirando al futuro para facilitar la gestión de las dietas la osi araba

pero conscientes de los beneficios de mantener la contratación unificada avanzar en la confluencia organizativa de la gestión de las cocinas para facilitar

tiene posibles cambios para futuros expedientes tramitando separadamente materias primas y fungibles o como posibilidad gestionar

está previsto avanzar hacia un responsable único de la gestión de la hostelería que facilite hacer más homogéneo el servicio de cocina de ambos hospitales de igual modo

que estaban en ambos hospitales y en consecuencia duplicados al producirse su fusión en una osi hablamos de recursos humanos laboratorios entre otros para ello se nombrará una jefatura única en el servicio de hostelería y un responsable de los contratos que impliquen a los dos centros y las dos cocinas

en reducir estas diferencias operativas por otra parte se trabaja en estandarizar las dietas

entiendo que se deben adecuar para cada tipo de paciente lo que se trabaja con dietistas endocrinos y los propios profesionales de hostelería adicionalmente y de forma complementaria como ya he mencionado el grupo de trabajo formado por la dirección económica financiera de osakidetza está analizando

la trazabilidad de estas peticiones de fungibles para realizar un informe detallado sobre la gestión de la hostelería llevada a cabo por la osi araba es decir aunque la osi

cuatro años se encuentra en un proceso de adaptación de servicios y los servicios de cocina han estado inmersos en esta transformación se están tomando medidas para mejorar la gestión también para evaluar los últimos años ser más eficientes

de ofrecer el mejor servicio a los pacientes azken finean hori da helburu nagusia

on bat eginda por último quisiera volver a remarcar que ni en la osi

se niega a mantener reuniones con cualquier grupo sindical o agente social

explicado todas las actuaciones que se están llevando a cabo en cada momento y además se han implantado sistemas

cuya finalidad principal es facilitar una mejor gestión esta ha sido precisamente la fuente

pero insisto sin un contraste supuestamente lo ha trasladado a la fiscalía eskerrik asko eskerrik asko murga andrea

una pregunta de esta índole pregunta sobre el ranking del monitor de reputación sanitaria elaborado por el instituto de análisis

como usted bien sabe es un ranking elaborado por profesionales y pacientes avalada por diferentes organizaciones un ranking en la que se utilizan

indicadores hospitalarios y es un ranking además que

nos ha vuelto a llamar la atención que los hospitales vascos no salen muy bien parados en este ranking hay que decir que en la misma primera posición año tras año aparece el hospital de la paz

repiten nueve hospitales y el primer hospital vasco que aparece es el galdakao

no ya el puesto que estamos en el número veintiséis y luego le diré por qué nos ha sorprendido

antes que nosotros pues hay otros hospitales que una pensaba que eran un poquito más modestos que los hospitales que tenemos

del país vasco por delante tenemos el hospital universitario de la

el hospital universitario reina sofía en córdoba el hospital universitario central de asturias el hospital regional universitario de málaga

pero es que además no solo es que este año aparezcamos en el puesto número veintiséis el primer hospital que aparece es el número veintiséis el de galdakao

en el treinta y tres el de cruces y el hospital universitario de álava el cuarenta y dos y luego hay que alejarse bastante para volver a ver hospitales

setenta y seis el hospital donostia pero es que llama la atención porque ya le digo que todos los años no aparecemos del veintitrés como apareció en el año dos mil dieciséis me gustaría señora consejera que no me despachara con las afirmaciones

y que me señaló que había infinidad de temas más relevantes para tratar en este parlamento

era cuestionable o que se utilizaban indicadores desconocidos ya le digo que en el puesto más arriba que hemos aparecido en los últimos años ha sido en el puesto veintitrés yo como ciudadana vasca le tengo que decir que sin duda no me conformo que creo que no se puede caer en esta cuestión

cuando somos la comunidad autónoma que más gastamos por habitante presupuestos

parece además que esta cantidad va a ser mayor en los próximos presupuestos que ustedes han pactado con podemos en donde el gasto por habitante es el mayor de todas las comunidades autónomas

euros conclusión creemos que este gobierno no gasta de forma muy eficiente

en una materia tan sensible como la salud a la vista está de los resultados que se obtienen en este ranking en donde año tras año aparecemos como pronto en

consejera desacreditar un ranking que ya está consolidado y por eso pues me parece que estos
resultados evidencian que se hace una mala gestión eskerrik asko garrido andrea

presidente andrea legebiltzarkideok garrido andrea en primer lugar me gustaría explicar ante esta cámara

que el monitor reputación sanitaria es un ranking de hospitales publicado por una empresa privada llamada merco una empresa que teóricamente analiza la reputación de las organizaciones sanitarias en base a dos ejes uno el reconocimiento que logra la organización sus servicios y sus profesionales

no muy bien conocida y dos valorando determinados indicadores de gestión que deben aportar las organizaciones a una empresa privada es decir

que es público pero con antelación a hacerse público y datos de cada organización y si no lo aportan quedan en peor posición por lo tanto señora garrido este estudio se trata de una iniciativa privada

a sectores como laboratorios y aseguradoras de salud respetamos este tipo de estudios y entendemos que puede tener utilidad para quienes la organizan y la financian pero se aleja totalmente de nuestro ámbito de actuación

de nuestro interés como servidores públicos somos los primeros interesados en poder ofrecer a la sociedad vasca un buen sistema sanitario y para ello empezamos con unos buenos presupuestos con una cantidad por habitante que nos parece la adecuada es lo que los vascos y vascas

para ser eficientes como muestran otras informaciones tienen una metodología conocida como puede ser el último sociómetro vasco la imagen de los servicios públicos entre los vascos y vascas

es muy buena o bastante positiva además

así el ochenta y cuatro por ciento de los encuestados de una muestra aleatoria de vascos y vascas representativa de toda la población

al interés de determinados agentes privados considera que los servicios de salud de euskadi funcionan bien herritarren iritzia da

egiten dugu por eso nosotros hablamos siempre de calidad de satisfacción de indicadores de estándares nacionales e internacionales de objetivos

pero siempre en base a datos rigurosos y contrastables y en esos rankings en los que son objetivos sí estamos a la cabeza estudios sobre el cribado de cáncer de cérvix a nivel europeo e internacional

ahí también estamos a la cabeza esos son los reconocimientos que realmente nos interesan

no apostamos por tener el mejor hospital del estado a nivel individual

apostamos por tener el mejor sistema de salud para toda la población con equidad y en ese ranking estamos a la cabeza eskerrik asko

consejeros consejeras compañeros y compañeras parlamentarios nekane murga consejera un placer siempre saludaros ayer estábamos varios médicos

que esperemos que se publique próximamente y

y a ver qué me dice y esta es la pregunta hay momentos en la vida que las organizaciones tienen oportunidades históricas van a entrar cientos de profesionales nuevos en osakidetza

uria jauna la ley cincuenta y tres barra mil novecientos ochenta y cuatro de veintiséis de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas resulta de aplicación al personal sanitario facultativo que presta servicios en osakidetza obviamente asimismo

el real decreto quinientos noventa y ocho barra mil novecientos ochenta y cinco de hogeita hamar de abril en el artículo unobatgarrena

se concreta que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño por si o mediante sustitución de un segundo puesto de trabajo cargo en el sector público salvo en los supuestos previstos en la misma y estos supuestos son los que se recogen en el artículo tres de dicha ley

así como usted ya sabe señor uria para el ejercicio de la segunda actividad también en el ámbito privado es indispensable una autorización de compatibilidad

es más podríamos decir que es habitual la autorización de compatibilidad para el desempeño de puestos de profesor profesora asociado o contratado universitario a tiempo parcial según la dedicación establecida en el convenio entre la upv

para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y docencia universitaria es habitual nos parece bien

me alegra que crean muchos facultativos médicos y profesionales como usted y yo en el olentzero

eskerrik asko señora consejera por la contestación efectivamente

el marco jurídico que discutimos ampliamente el trece del once del dos mil diecisiete en la comisión de salud el ciento tres de la constitución que habla de la imparcialidad del ejercicio de funciones públicas

de la ley de incompatibilidades el decreto quinientos noventa y ocho barra ochenta y cinco de desarrollo reglamentario

tenemos un amplio marco jurídico de hecho discutimos en aquella comisión de salud

veamos madrid extremadura y cataluña no cumplen nada de la ley

madrid dice que se puede trabajar en la privada no más del tiempo de la mitad de la pública galicia andalucía y asturias aplica la incompatibilidad con complemento de exclusividad

estricta a los jefes de servicio que trabajan en la pública en relación con la privada

y nosotros estamos cansados de ver páginas web

de centros del sector privado y del sector concertado con nombres de médicos en euskadi que trabajan en osakidetza estamos cansados que la propaganda de los centros privados como hospital quirón o el imq entre otros además de aseguramientos

a médicos que trabajan en el sector público jefes de servicio estamos cansados que los propios pacientes nos comentan una y otra vez que tienen los mismos médicos cuando van al sector público y privado dando lugar a todas las corruptelas que usted ya conoce perfectamente y parasitismo receta aquí receta allá placa aquí placa allá tac aquí etcétera etcétera y usted habla bien de la autorización de docencia fíjese

tendremos que hablar de qué facultad de medicina tenemos en euskadi cuando la mayoría de su plantilla está a tiempo parcial o preparamos una facultad de medicina potente de calidad y eficiente para competir con la nueva facultad de medicina que van a montar los jesuitas en deusto o nuestra facultad de medicina se va al el punto de vista competitivo porque la mayoría de su plantilla

por lo tanto los intereses de muchos de nuestros amigos profesores catedráticos de la facultad de medicina del país vasco tienen dobles intereses su puesto de trabajo en nuestros centros públicos y su puesto de trabajo como profesores

hemos planteado que es una oportunidad ordenar lo que tenemos desordenado

que el mercado está muy complicado y lo que no tengamos capacidad de blindar hoy de
blindar a nuestros profesionales hoy eskerrik asko uria jauna los perdemos el día de mañana seguro como usted sabe murga andrea

a fin de hacer cumplir lo previsto en la ley de incompatibilidades en el momento de la toma de posesión del destinado del destino adjudicado

firma una declaración jurada una declaración en la que manifiesta y leo textualmente que no viene desempeñando ningún puesto o actividad

delimitado por el artículo uno de la ley cincuenta y tres barra mil novecientos ochenta y cuatro de veintiséis de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas ni realiza actividad privada incompatible o sujeta

como es el caso de las concertadas además añadiré que esta declaración jurada deriva del cumplimiento del requisito establecido en la base seis punto dos

por ello señor uria en el caso de que en el momento de la toma de posesión el o la profesional desempeñe alguna actividad sujeta a la ley de incompatibilidades debe ponerlo en conocimiento de osakidetza debe comunicarlo y solicitar la oportuna

o no bajo su responsabilidad y así cumpliendo la ley

barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias presidenta

señorías buenas tardes bien esta es una interpelación en relación con algo que tenemos reciente

presentó un proyecto de ley sobre patrimonio cultural el parlamento vasco pues lo analizó lo estudió y por ley seis barra dos mil diecinueve de nueve de mayo pues tenemos una ley de patrimonio cultural vasco y en ella

un órgano se constituye y se crea un órgano que tiene que ser importante

en relación con su organización su funcionamiento sus funciones como consulta como asesor del gobierno de las instituciones en relación con lo que tiene que ver con el patrimonio cultural vasco está claro que ya le hizo también el señor estarrona alguna pregunta

en la redacción de este decreto o de esta disposición reglamentaria como de otras de la ley para nosotros ya lo dijimos también en la tramitación de bueno del proyecto de ley

en comisión y en el pleno era importante y es importante la composición

la presencia en el consejo de expertos de los diversos recursos vascos ligados a muchas cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural

del patrimonio y desde luego ligados al estudio del patrimonio

al conocimiento del patrimonio de ese patrimonio que lógicamente donde adquiere una nueva expresión el patrimonio inmaterial lógicamente con el mueble e inmueble

nuestras claves y nos interesa especialmente que ese instrumento vaya bien mi grupo

muy sorprendido en la tramitación del proyecto ley muy sorprendido cuando bildu le hizo un favor

es decir el proyecto de ley establecía en el artículo cuatro

lo que era el consejo del patrimonio cultural vasco y en lo que

su composición estaba integrado por los siguientes miembros

que iba a ser del gobierno la vicepresidencia iba a ser el gobierno vocal correspondiente también a entidades

estaba bien nutrido el gobierno la dirección del gobierno vasco con competencia

pues la diputaciones asociaciones de municipios la universidad del país vasco colegio oficial vasco navarro personas de reconocido prestigio

inmaterial es decir definía

además la presidencia podría nombrar un máximo de cuatro miembros entre personas técnicas especialistas expertos de que todos tendríamos y eso

hablar de esta cuestión y de tratar de mejorarla nosotros presentamos unas enmiendas también pues para mejorar

tiene características de expertos en cuestión de patrimonio cultural deusto

historia literarias todas una serie de cuestiones y de historia

un factor integrante en la composición o también echábamos de menos un representante de diócesis vascas en relación con y sus expertos en las diócesis tienen expertos en patrimonio cultural

de la mayoría del patrimonio cultural que hay en este país y sin embargo no se hizo ese debate sino que el debate que se hizo es

del consejo vasco de patrimonio cultural que lo decida el gobierno

y esos pasos atrás que da el parlamento y el trabajo legislativo pues son pasos atrás es decir podríamos haber hablado de cómo enriquecer esa composición

del consejo de patrimonio cultural vasco pero en cualquier caso

la tiene el gobierno bien a mí me gustaría preguntarle señor consejero porque está ahí el artículo cuatro del consejo

es decir se va a reglamento la composición organización y funcionamiento y funciones

tal la composición entonces por reglamento también todo lo que

se podían haber definido por la ley se van ahora a reglamento con lo que es una rebaja legislativa curiosa pero en cualquier caso nos interesa saber cuáles son los propósitos

en relación con la definitiva aprobación vía decreto de la composición organización funcionamiento y funciones del consejo del patrimonio cultural de la comunidad autónoma vasca está bien claro que ustedes ya tenían una previsión y ya tenían todavía no está el decreto después de estos meses

tenían una previsión porque lo habían manifestado en la redacción del proyecto de ley nos gustaría saber cómo está ese qué enfoque le están dando a la composición y

de la comunidad autónoma del país vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

el parlamento vasco como ha dicho y como nos ha recordado usted aprobó

y contó además con el respaldo de una amplia mayoría en esta cámara y fue así porque los grupos parlamentarios entendieron

que era necesaria una actuación una actualización y una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico para incorporar al mismo la evolución conceptual que

experimentado estas últimas décadas euskadi fue pionera en su día en regular esta materia con la ley de mil novecientos noventa

para una gestión integral del patrimonio cultural desde su identificación y documentación

la aprobación de la ley creo que fue un hito importante para seguir avanzando en el conocimiento el tratamiento y la transmisión de nuestra herencia cultural y bueno

de sobra conocidos pero porque considero que es una forma de responderle

aspectos de la misma la primera la que hace referencia los órganos competentes en la gestión del patrimonio cultural y en ese sentido me gustaría precisar cuáles son las competencias que corresponden a cada nivel institucional

le corresponde la coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas en materia de patrimonio cultural la declaración de los bienes culturales

la elaboración y el mantenimiento actualizados del inventario

la realización del informe preceptivo sobre las normas y planes que afectan al patrimonio cultural el impulso a las medidas económicas de fomento para su puesta en valor

para sí o para otras instituciones la divulgación del patrimonio cultural vasco y la promoción de acuerdos y relaciones con otras comunidades autónomas administración general del estado instituciones europeas y organizaciones internacionales a las diputaciones forales la ley les reconoce la competencia

la autorización de intervenciones sobre bienes culturales protegidos

de actuaciones realizadas en bienes integrantes del patrimonio la realización del informe preceptivo propio a la resolución del expediente de declaración de ruina el impulso a las medidas económicas de fomento para su conservación y restauración la regulación

y la divulgación del patrimonio cultural localizado y por último a los ayuntamientos les corresponde redactar y gestionar los catálogos urbanísticos de protección

adoptar medidas para evitar daños en el patrimonio en caso de ruina inminente y fomentar y divulgar el patrimonio cultural del municipio

estas son todas las materias que abarca la protección y el desarrollo del patrimonio y estas son las instituciones y estas son

por lo tanto la ley y creo que ese era uno de los aspectos más importantes que

aborda la protección del patrimonio como una materia que precisa una gestión integral

se produce de acuerdo a las competencias y la coordinación entre las diferentes

por lo tanto la gobernanza compartida es la base

en ese sentido y como órgano asesor y para mejorar esa gestión de las competencias que a cada nivel institucional corresponden la ley crea también

interinstitucional que deberá favorecer el intercambio de información y colaboración proponer criterios comunes

proponer medidas de coordinación y promover una cooperación efectiva con otras administraciones en aspectos como la ordenación del territorio el urbanismo la vivienda la industria el medio ambiente el turismo o la educación y como usted ha dicho o ha recordado

vía reglamentaria y por otro lado establece la creación del consejo de patrimonio cultural vasco que es también un órgano consultivo participativo

y puede invitar también a profesionales del sector debe asesorar a las administraciones públicas en esta materia emitir informes para el gobierno sobre propuestas de declaración de los bienes de protección especial o emitir informes previos a dejar sin efecto declaraciones de bienes culturales

ya que efectivamente la creación de este órgano mediante un reglamento es algo que incumbe al gobierno y que como gobierno debemos hacer usted pregunta sobre los propósitos de su composición y funcionamiento y yo debo referirme

especialista o por representantes de los sectores profesionales que actúan en el ámbito del patrimonio cultural y la ley también dice que debe contar con un soporte técnico suficiente para sus tareas que se debe organizar en plenario o en comisiones y que tendrá una composición equilibrada de hombres y mujeres por lo tanto me he remitido

el marco en el que la dirección de patrimonio cultural se está moviendo en los trabajos internos que está realizando para elaborar el documento

son tareas de carácter interno estamos en ello las tareas de planificación de la dirección de patrimonio se iniciaron el uno de octubre y está prevista su finalización para dentro de un año aproximadamente como

en la respuesta que nos planteó el señor estarrona en nombre de eh bildu el pasado quince de octubre eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

respuesta está bien claro si era necesario un nuevo instrumento

que habían quedado obsoletas y otras que era necesario regular porque no estaban definidas y nosotros así lo reconocíamos

de totalidad por nuestra parte y en ese sentido nos lanzamos a un debate en

en comisión un debate parlamentario y esa es nuestra aportación no también ha hecho un repaso

por la ley y por las competencias de las

a las diputaciones forales y a los ayuntamientos en relación con una cuestión que es clave nuestro patrimonio cultural y su preservación y su regulación

y desde luego pues nos quedábamos y como finalmente y por eso era el objeto de nuestra interpelación en el consejo vasco

porque iba a unir esfuerzos porque iba a ser un punto de vamos aparte de esas labores de asesoramiento de emitir informes no nos cabe ninguna duda de que la de que la presencia la presencia de expertos en relación con esos informes

iba a ser importante y por eso estaba muy bien que se hubiese determinado en la ley y éso es la que

de un consejo importante rebajar a través de una enmienda de bildu

gobierno establecía a una exigencia administrativa hubo una cosa que se quedó sin resolver en los trabajos de la comisión

nosotros teníamos algunas enmiendas es decir me gustaría saber si las ha valorado usted como efectivamente el gobierno y los grupos que apoyaban al gobierno estuvieron encantados de la enmienda de bildu porque en vez de regularlo por ley el consejo lo regulaba y lo nombrado el gobierno pues y entonces asumieron inmediatamente

con lo bueno que tenía esa ley porque enriquecía la ley el hecho de establecer la composición

ahora no ahora lo hará el gobierno o sea eso es bueno para el gobierno

algunas cuestiones nosotros planteábamos un par de cuestiones que tenían que ver con

que podían participar en la composición de ese consejo de ese consejo de patrimonio cultural de euskadi está bien claro nosotros hablábamos de la universidad de deusto porque ustedes hablaban

la universidad del país vasco y está bien claro que la universidad de deusto está íntimamente ligada académicamente ligada

con el conocimiento el estudio de nuestro patrimonio cultural y nosotros estábamos también habíamos hecho una propuesta que no se debatió porque efectivamente se asumió la iniciativa y

incluir también algún miembro experto de las diócesis

de vitoria de san sebastián de bilbao de los obispados que lógicamente tienen mucho que decir en materia de patrimonio cultural porque vuelvo a decir la mayoría del patrimonio cultural en términos generales de este país es de la iglesia católica

esa cuestión si ustedes están valorando también ese planteamiento

en el trámite porque era un planteamiento que en algún momento vi alguna disposición de aceptarlo lo que pasa que luego se cambió por la asunción de la enmienda de bildu que rebajaba

nos sorprendió en ese caso y en cualquier caso el hecho de rebajar esa exigencia legal que teníamos

administrativa como nos sorprendió también mucho el hecho de que señor consejero esto ya casi es un pequeño desahogo el hecho de que definíamos el patrimonio cultural vasco de una manera amplia no patrimonio arqueológico paleontológico

artístico cultural histórico

pero fuimos incapaces de meter el patrimonio religioso y fíjese usted

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok señor barrio

no conseguía entender cuál era la razón última de la interpelación ahora me lo ha aclarado usted y le agradezco la información que me ha suministrado

y las otras instituciones mostrarán un desinterés absoluto por el patrimonio inmueble o mueble que pertenece al iglesia católica y creo que

creo que no tiene usted razón la iglesia tiene bienes muebles

familias u otro tipo de instituciones en este país tiene bienes inmuebles como otras familias empresas o instituciones y el gobierno atiende a todas además en el caso de la iglesia católica

pero bueno seguiremos trabajando por la conservación del patrimonio

la oportunidad sí me gustaría decir que

no ha restado ninguna de las tareas que ya venía ejecutando el equipo de trabajo de la dirección de patrimonio del gobierno pero ha añadido un montón de nuevas tareas

a las obligaciones que van a derivar de esa ley y esto exige una planificación del trabajo exige también definir las tareas que se deben acometer y ya que me da usted la oportunidad le voy a dar una explicación de cuáles son

en las que en estos momentos está trabajando este equipo de patrimonio estamos en la elaboración del reglamento del órgano institucional que también prevé la ley estamos en la regulación del registro

estamos en la regulación del registro de bienes culturales de protección básica y se están iniciando las tareas para el desarrollo referido a la protección y difusión del patrimonio inmaterial una tarea y un ámbito que es apasionante

y nuevo también es mi voluntad que todos los aspectos referidos a esta nueva ley se desarrollen se desarrollen con la mayor

y el órgano que también debemos abordar en primer lugar debe contar creo yo con el beneplácito de los diferentes niveles institucionales a la hora de identificar a los miembros que nos van a acompañar en este consejo porque al final son las instituciones

y competentes en esta materia de todas formas también de cara a la composición de ese órgano es preciso que conozcamos otras opiniones

organizamos el pasado mes de mayo desde la dirección de patrimonio una sesión abierta dirigida al personal técnico de los ámbitos de la cultura la arquitectura y la arqueología

y los ayuntamientos donde presentamos los nuevos aspectos de la ley y también

en todo tipo de foros con ese mismo objetivo también se ha establecido una labor de coordinación con el departamento de ordenación territorial medioambiente y vivienda

que el desarrollo de la ley requiere y también estamos en relaciones con los ayuntamientos para completar el inventario de protección básica que como usted sabe pues se presenta como un objeto de trabajo

por lo tanto vamos a seguir trabajando para ver si podemos cumplir con la periodificación que se ha establecido para la tarea

vamos a intentar aceptar sugerencias y ser abiertos en la definición de los miembros que deben completar o formar ese comité ese consejo consultivo y bueno espero que

gracias señora presidenta buenas tardes a todos efectivamente en el polideportivo municipal de gobelas en getxo y con motivo del setenta aniversario de la declaración universal

en la que a cada artículo de la declaración se acompaña una viñeta el artículo cinco de este

aparecen unos policías vestidos de uniforme armados con porras y escopetas y riéndose mientras leen un libro que se titula derechos humanos a nuestro juicio no sé al suyo señora consejera dicha viñeta es absolutamente ofensiva y no se corresponde con la actuación de nuestra policía

el odio y la violencia contra el colectivo la exposición parece que está patrocinada por el gobierno vasco pero aunque no lo estuviera usted debiera haber dicho algo por ello

que salga y nos explique por qué no ha hecho nada por qué no ha levantado la voz para pedir

ertzaintza aparece retratada como mamporrera y torturadora por qué no ha movido un dedo para defender

y no sé si me va a poner la excusa de la libertad de expresión y ya le anticipo que a nuestro juicio esto no va de la libertad de expresión

que en muchas páginas webs se está identificando en esa viñeta a la ertzaintza esto va señora consejera de que no se puede mirar para otro lado cuando se desacredita la trayectoria de la ertzaintza

para otro lado lo que se está haciendo es alimentar la estrategia de descrédito y de insultos que desde determinados sectores de esta sociedad que todos identificamos de manera clara

señora consejera ese señalamiento a la ertzaintza no se puede consentir y usted tiene la responsabilidad de salir a defender a los agentes

redoblada porque ustedes sembraron vientos y ahora recogen

avaló que la ertzaintza tenía que reforzar su compromiso con los derechos humanos como si no lo hubiera tenido desde siempre y usted no dijo nada

sí solamente por valoraciones personales sin base legal jurídica ni denuncia alguna y usted no dijo nada el señor otegi por llamarle de alguna forma en la televisión vasca insultó a la ertzaintza llamándoles

no dijo nada ese compadreo con bildu por cálculos políticos y electorales esa manera de hacer política y de ejercer sus responsabilidades nos lleva a este tipo de situaciones a que se admita como normal que se insulte a nuestra policía que usted

pasa que miles de agentes de la policía salen a la calle a hacer su trabajo con profesionalidad con rigor con seriedad con responsabilidad

ninguna gracia que les insulten que les acusen de torturadores y de que se ríen de los derechos humanos por ello señora consejera ejerza con su obligación

defienda a los agentes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado porque es una obligación democrática de todos pero mucho más de usted hágalo por responsabilidad política institucional pero también por empatía le parece normal que se considere que la policía se ría ante los derechos humanos le parece normal que con esas risas lo que se quiera mostrar es que la policía tortura de manera sistemática no tiene nada que decir no va a levantar la voz

esa foto de la exposición señora consejera debiera de haberlo hecho no solo por responsabilidad institucional y empatía sino fundamentalmente para estar a la altura

eskerrik asko mahaiburu andrea señora llanos me pregunta por una viñeta de una exposición con conmemorativa divulgativa sobre la declaración universal de los derechos humanos

remarcar la exposición conmemora el setenta aniversario de la declaración universal de los derechos humanos entre el cuarenta y ocho y dos mil dieciocho la crearon con esa finalidad es un proyecto de creatividad artística de exposición sostenible

la exposición como usted ha dicho cuenta con el aval del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos y exhibe permanentemente en la página web de cartoon movement

puede usted observar como otros muchos proyectos de similares características con otros motivos también se exhiben en esa página web de la que cualquiera podemos descargar

sobre la seguridad alimentaria el universo de la basura sobre el día de los océanos en fin

se cita a ninguna organización en concreto a ninguna

el trabajo sobre la participación política

ha plasmado su visión particular sobre un derecho humano concreto y evidentemente yo creo que en esto estará de acuerdo conmigo en que es imposible que todo el mundo esté de acuerdo y comparta una visión particular

porque la visión del mundo también depende del entorno en el que cada cual viva de la realidad en la que cada cual

esa que aparece en la viñeta es la idea de policía que tiene el ilustrador brasileño pues quizás sí quizás sí

la generalidad es una exposición insisto avalada por el alto comisionado de naciones unidas es una exposición itinerante es una exposición que se

en varios lugares del mundo que está abierta como le decía antes permanentemente es una exposición en la que no hay ningún artista vasco que hay una representante española pero también le digo que no voy a ser yo quien ni la viñeta de ese autor de ese ilustrador y tampoco voy a avalar incluso el gusto que ha tenido quien ha seleccionado esa viñeta lo que sí me preocupa es que el criterio de ese brasileño que en ese criterio que expresa este artista brasileño vea alguien el reflejo

yo no lo veo ahí yo no lo veo ahí le he dicho antes no creo en las generalidades y yo no estoy viendo ahí el reflejo
de la ertzaintza espero que usted tampoco lo vea eskerrik asko eskerrik asko beltran de heredia andrea

once de los controles por lo menos de los que la

se produjeron nueve como ha comentado usted antes entre febrero y agosto y dos más

y en agosto todos estos controles no comunicados a excepción de uno de ellos tienen una característica común se han desarrollado la mayoría de ellos en localidades cercanas a la frontera en localidades cercanas a irún o en el propio irún pero

queja nuestra falta de comunicación al ministerio al ministerio de interior y desde ese momento ha habido siete controles más que

todos los controles comunicados y no comunicados corresponden a la guardia civil no tenemos conocimiento ni hemos detectado ninguno que se haya producido por la policía nacional y es verdad que las fuerzas de seguridad del estado

el deber de comunicar los controles es una cuestión además en la que cada cierto tiempo como hemos venido repitiendo nos vemos en la obligación de recordar esa necesidad de comunicarnos y de comunicar

motivación y si la motivación efectivamente es acorde con las competencias que

y seguiremos haciéndolo cada vez que sea necesario de momento lo que le puedo decir es que en el segundo semestre de este año los canales de comunicación han
funcionado cosa que no ocurrió en este primer semestre de del año eskerrik asko eskerrik asko beltran de heredia andrea

bai eskerrik asko beltran de heredia andrea efectivamente hay un problema de comunicación

verdaderamente grave que es la persistencia de existencia de estos controles veintisiete me puede decir no es una gran cantidad pero vuelvo a decir

cero control de la guardia civil en este país porque además llevándolo a su terreno es el propio estatuto

en qué casos se podrían llevar a cabo estos controles y hay tres requisitos

por propia iniciativa cuando estimen que el interés general del estado está gravemente comprometido siendo necesaria la aprobación de la junta de seguridad y me imagino que ni existe este riesgo ni en existe la aprobación de la junta de seguridad

podrá intervenir bajo responsabilidad exclusiva del gobierno de madrid dando este cuentas a las cortes generales y me imagino que ni hay una especial urgencia ni se está produciendo esa dación de cuentas en frente de las cortes y entonces considero que es una intervención ilegítima

y eso trae los problemas uno la arbitrariedad y el trato denigrante que se ofrece a la ciudadanía en esos controles pero también considero que disputa su autoridad y mina esa visión que usted tiene de ertzaintza como policía integral porque en cierta manera la supedita o la subordina

nosotros vamos a seguir haciendo controles a la brava y

sino que en otros ámbitos también están entrando como es en la asunción de rescate marítimo

que ahí está entrando en servicios de medio ambiente que

y a mí eso me preocupa esa guardia civil en expansión yo quiero saber si su departamento va a poner

norberari ez dagozkion eskumenetan eta esku hartzea si no recuerdo mal la pregunta de hoy iba sobre el tema de los controles no comunicados ya le he detallado cuál es esa situación una situación que se ha corregido que está normalizada desde agosto

distintos cuerpos policiales y de seguridad es absolutamente necesaria y buena muestra de ello es el operativo policial que acabamos de llevar a cabo esta misma semana entre la policía nacional de

positivo en cuanto a la incautación de una tonelada de hachís y cincuenta kilogramos de

información y coordinación sí siempre pero cualquier intento de invasión competencial

no tenga ninguna duda no tenga ni la más mínima duda de que defendemos y defenderemos nuestras competencias y daremos la batalla política allí donde haga falta y hasta donde haga falta eskerrik asko